nuestro grupo está a favor de esta ley por si no ha quedado claro está a favor de esta ley

si bien es cierto que cuando esta ley se presentó en el parlamento fuimos muy críticos con su contenido

nuestro grupo se reivindica como una fuerza útil

de mejorar la vida de la gente nuestro grupo se reivindica como un grupo

en que nuestro país aborde la necesaria transición energética y creemos que esta ley va a permitir hacerlo

en el ahorro y la eficiencia energética por eso cuando llegó esta ley fuimos críticos pero

en mejorar a través de enmiendas su contenido en llegar a un acuerdo y no solamente en llegar a un acuerdo con el gobierno y fuimos los primeros en llegar a un acuerdo con el gobierno

en extender este acuerdo al resto de fuerzas de la cámara porque no hemos creído nunca que la mejor forma de aprobar una ley sea de forma restrictiva sino lo más amplia posible

la única de las maneras en las que vamos a poder desarrollar un modelo económico diferente no solamente ahorramos energía

no solamente ahorramos energía para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles que importamos que también

más moderna para hacer una economía más moderna más justa y más sostenible y frente al uso intensivo de energía que tienen casi todas las economías

que nuestra economía que la economía vasca se caracterizase en un futuro próximo por hacer un ahorro intensivo de energía en vez de un uso intensivo de energía porque

la economía vasca nunca va a tener energías fósiles por mucho que el gobierno las siga buscando en el subsuelo no vamos a tener energías fósiles y posiblemente tampoco

la campeona de las energías renovables por lo tanto no nos queda otra que ser campeones en ahorro y en eficiencia energética y por eso nuestro grupo está

varios pilares que habría que destacar y voy a emplear muy poco tiempo en destacarlos es una ley efectiva es una ley ambiciosa es una ley vinculante y es una ley aplicable

hemos conseguido a través de la negociación con el gobierno que sea una ley que se pueda

trasladar a todo el sector privado a la industria al transporte al comercio y a la vivienda es una ley ambiciosa porque tiene objetivos concretos a cumplir en plazos concretos quiero destacar tres de ellos en diciembre de dos mil treinta

abandonará el uso del gasoil para usos energéticos abandonaremos el gasoil para usos energéticos esto es un hito de país ahora que se está diciendo que no podemos prescindir del gasoil para otros usos con esta ley en diciembre dos mil treinta el gasóleo para usos energéticos en viviendas

será historia en dos mil veinte

públicos que adquieran nuestras administraciones tendrán que ir propulsados por combustibles alternativos y hoy que se está diciendo que no podemos prescindir del gasoil nuestros vehículos

todos todos nuestros vehículos públicos serán con combustibles alternativos y en dos mil treinta el treinta y cinco por ciento del consumo energético las administraciones públicas tendrán que reducir en un treinta y cinco por ciento su consumo energético y un sesenta para el dos mil cincuenta

nuestras fuentes de energía esta ley deja claro que para dos mil cincuenta vamos a consumir la mitad de la energía que consumimos

pero además esta ley es aplicable porque tiene un régimen sancionador cosa que no tenía la primera ley

y en esto tenemos que darle las gracias también a las aportaciones que han tenido otros grupos especialmente euskal herria bildu tiene un fondo de financiación

las inversiones municipales de cien millónes de euros es una ley aplicable porque tiene dinero para aplicarse por detrás por lo tanto tenemos una ley

efectiva ambiciosa vinculante y aplicable que podría ser mejor

que este parlamento no deja de sorprenderme ha estado a punto de pasar algo inaudito que el único grupo que presentó una enmienda a la totalidad iba a ser el único que bajara en el turno de defensa

consejera señorías señores consejeros también desde el partido popular nos hemos abstenido

de las administraciones públicas vascas como se llamaba hasta hace un momento ahora a partir de esta aprobación y por las enmiendas incorporadas se titula

fue aprobado en ponencia dada la modificación del ámbito de aplicación

el transporte para el grupo popular aquí lo hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones

incidir en la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética como bases para la transición energética porque se ha demostrado que son alternativas

opciones a la hora de alcanzar los objetivos de descarbonización esta ley contempla medidas para el impulso de la eficiencia energética en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero

ejemplarizante en materia de sostenibilidad energética entre otras cosas porque la directiva europea así lo exige a partir del uno de enero de dos mil diecinueve para las administraciones públicas

privado para enero dos mil veintiuno no compartimos el procedimiento ni el método innovador utilizado en el trámite de este proyecto de ley aunque luego ponemos algodones y parece que no ha pasado nada no este tránsito

no lo pasamos no nos gusta no nos parece democrático y no nos parece que se pueda repetir esperemos que nunca se repita pasar de un proyecto cuyo ámbito de aplicación eran las administraciones públicas vascas a un proyecto

como se ha dicho aquí nos parece que requiere de un análisis mucho más profundo

disposiciones finales en las enmiendas incorporadas ha pasado

cinco disposiciones finales estas incorporaciones no cuentan con el criterio del gobierno no sabemos lo que opina el gobierno de esto por ejemplo por ejemplo pero es que

y lo dijo el señor otero en la enmienda de totalidad desconocemos cuál es la situación de cada uno de estos sectores previa a la ley y qué dificultades tiene para adaptarse tanto sectoriales como económicas cien millónes de euros yo no sé si son pocos o muchos no

ese fondo es bueno es suficiente no lo sabemos un parque de edificios descarbonizado en el horizonte

a la vez que le exigimos el mantenimiento de un papel impulsor del crecimiento sostenible y además mantener el empleo esto realmente

hablamos de financiación pero décimos hombre las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias financiaran y si no lo financian qué pasa el que no cumple multa oiga mire nuestras enmiendas

presentado un tercio de la ley que hoy se ha aprobado y el resto no hemos podido entrar por lo tanto yo agradezco mucho el tono que han tenido

nos han incorporado algunas de nuestras enmiendas otras se han transado

a la coordinación interadministrativa que es interdepartamental y también entre las propias administraciones en los propios departamentos

no han tenido bueno ese no nos las han aceptado ya trabajaremos en ese ámbito y seguramente más pronto que tarde tendremos que insistir en que eso pues es necesario como le decía mire nosotros creemos que el texto ya veremos si es bueno o no ya veremos si puede cumplir o no

a nivel del gobierno de españa pues van en contra de esta ley por lo tanto a ver como conjugamos y articulamos todo eso nosotros

pero creemos que merece una abstención por nuestra parte tanto el trámite como las oportunidades que como grupo hemos tenido para poder incorporar a esta ley
el criterio del grupo popular nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

el partido socialista ha emitido un voto a favor a este proyecto de ley porque considerábamos como consideramos en el principio que es una ley necesaria

y porque además era una ley demandada y absolutamente exigible además

de la que han hablado todos los portavoces es una ley que apremia a los gobiernos euskadi es una comunidad autónoma con unos datos de dependencia creo que más que preocupantes

y por lo tanto el debate también está encaminado a hablar del modelo es importante hablar de la producción del consumo y de la demanda

inicialmente como decía la señora lópez de ocariz tenía un objeto más concreto

pero la ley aprobada hoy es más ambiciosa con una afección superior a la inicialmente planteada como dijimos en septiembre del diecisiete cuando se debatió este asunto por primera vez

sin olvidar el componente ambiental mediante la implantación de energías renovables es más que importante señalar el apoyo casi unánime de esta cámara a esta ley pocas veces un asunto de energía une la demanda de grupos parlamentarios tan diferentes y parece que es un punto de partida para futuras iniciativas relacionadas con este asunto un pacto de país del que hablamos hace unas semanas

a trabajar por una política energética común que mirará al futuro y que debe tener en cuenta las diferentes normativas europeas y que apostara por un modelo más limpio y más eficaz nuestro voto favorable estaba más que justificado desde un comienzo este proyecto de ley lo puso en marcha el gobierno de patxi lópez aunque se ha mejorado y completado esta legislatura

era una ley necesaria e imprescindible y ha incorporado a casi todos los partidos de la oposición

y a partir de aquí será un paso demandado que pudiera concluir en un gran pacto por la energía una vez aprobada esta ley

para que a partir de aquí también euskadi pueda ser una comunidad autónoma

mucho menores a los que tenemos hoy por tanto a partir de hoy solo queda empezar a trabajar nada más muchas gracias eskerrik asko

becerra jauna otero jauna incluso la señora lópez de ocariz que se nos acaba de descolgar también muchas gracias

eskerrik asko bihotzez hace casi dos años que este parlamento recibió esta ley una ley que se ocupaba única y exclusivamente de las administraciones públicas

capacidad y mucha para ahorrar energía y debía asumir su función de liderazgo para acometer las iniciativas que este pueblo debía llevar a cabo en materia de eficiencia energética

para sentar las bases de un crecimiento sostenible en una economía descarbonizada y en esta coyuntura debíamos pasar a la acción y dar un paso decidido hacia la transición

este cambio de modelo es una oportunidad que no debíamos ni podíamos desaprovechar y creo que a futuro seguimos en las mismas ni debemos ni podemos desaprovechar esta oportunidad que se abre ante nosotros y nosotras tras estos dos años hoy hemos aprobado un texto mucho más ambicioso

una ley que será determinante y clave para la construcción de un futuro sostenible con beneficios económicos sociales y ambientales para el bienestar de la sociedad vasca

de estímulo para mejorar los niveles de eficiencia energética y cuyo fin es lograr la implicación de todos y todas

ejemplarizante la administración general las diputaciones forales y los ayuntamientos tienen por delante una tarea tan ardua como apasionante una tarea

para las que se constituirá una herramienta financiera que no un fondo que superará los cien millónes de euros y que facilitará las inversiones derivadas de esta ley en la administración local una herramienta que se irá reconstituyendo continuamente por medio del retorno de las ayudas en función de los retornos derivados del ahorro

que como país debemos encarar sin demoras hace dos años que venimos hablando de la necesidad de construir un pacto de país

estoy convencido de que hoy ponemos la primera piedra del mismo

hacia un nuevo modelo energético porque la lucha contra el cambio climático es una de las principales motivaciones para actuar en el área de la sostenibilidad energética y debemos reducir a corto plazo la dependencia de las fuentes de energía fósiles y yo añadiría debemos reducir la dependencia así en general ahorro y eficiencia son la otra pata de este camino esta transición requerirá actuaciones que permitan cambiar patrones y modos de consumo

este cambio puede y debe producirse mientras se mantiene un cauce razonable de energía para los usuarios y se garantiza en todo momento la seguridad del suministro

señoras y señores es el siguiente reto al que debemos hacer frente bukatzera noa

gracias señora presidenta señora consejera consejeros señorías presento esta moción consecuencia de la interpelación que planteábamos a la señora

en álava en el país vasco la realidad a día de hoy es que

para el sector remolachero azucarero y siendo totalmente dependientes de la industria

la ruptura del acuerdo que mantenía la relación interprofesional entre el sector productor y la industria la ruptura del acuerdo por parte de la industria azucarera roto un poco la trayectoria que estaba llevando la producción en este tránsito eliminarse las cuotas de producción como decía

finalizado el sistema de cuotas se formalizó un acuerdo

para las campañas dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil dieciséis dos mil diecisiete todavía se mantuvieron la prórroga de cuotas

ya sin cuotas que regula como decía esas relaciones recíprocas

europea y española entre otras cosas en este acuerdo se fijaba los precios y se decía y se dice que los precios ofertados podrán ser revisados de común acuerdo por las partes si se altera sustancialmente el compromiso

del acuerdo es unitaria e indivisible y que tendrá validez para las cinco campañas sucesivas

comprado la realidad es que azucarera de manera unilateral propone una bajada del precio

sin concurrir las circunstancias que en el acuerdo se fijan para esta situación esta bajada supone un recorte de un veinte por ciento

menor producción una reducción del treinta por ciento dicen que es de las ultimas veinte campañas la peor por lo tanto estamos en una situación de producción

porque las altas temperaturas y la humedad ha provocado que haya más enfermedad con lo cual la bajada de la producción ha sido importante ustedes saben perfectamente que desde la unión europea se han eliminado cantidad de fitosanitarios que antes se podían utilizar para tratar las enfermedades hoy no se tratan eso va en merma de la producción

justo en esta campaña que hay merma de producción la industria hace ese recorte

por tonelada con lo cual la situación como se pueden imaginar es crítica es crítica alarma al sector

total en estos momentos en estas fechas es cuando los productores de remolacha compran la semilla que luego van a sembrar

es decir ahora hacen la planificación de su producción

tienen que sembrar cebada y la cebada se siembre en marzo por lo tanto están en un momento muy crítico de decisión hay una fase como se dijo en la interpelación la empresa y las organizaciones agrarias que se ha fijado para mayo pero la campaña como les digo se decide ya ahora se comprar la simiente y si no se compra no se siembra y si no se siembra

baja la producción con lo cual probablemente pueda decidir que miranda a la cierra o que sigue bajando el precio con lo cual la situación requiere de

tenemos que pensar en la siguiente campaña cómo generamos certidumbre al sector para que tome una decisión

sabiendo a lo que se expone y cómo la administración puede ayudar o contribuir a que esa producción y la relaciones que está teniendo el gobierno vasco como aquí se expuso con azucarera confluyan en que se pague un precio adecuado por lo menos que no haya esas pérdidas

en el precio de la remolacha y como coincidimos con la señora consejera

es un poco tarde y además hay que hacer algo más para dar certidumbre

nos han insistido los productores lo importante que es que el gobierno les transmita las posibilidades que están valorando para la próxima campaña y cómo afrontar el futuro en este momento están bloqueados y es imprescindible para nosotros reunión cuanto antes los productores han leído la interpelación y lo que la señora consejera dijo aquí pero necesitan alguna concreción

el gobierno está provocando o está intentando que

haya en la agenda una reunión con el sector y poder bueno aquello que la consejera dijo en esta cámara lo puedan poner encima de la mesa y concretar algunos aspectos nosotros hemos llegado bueno presentamos una moción los grupos del gobierno y también

presentaron enmiendas creo que hemos confluido todos en un texto

por lo menos los productores lo han leído les parece bien más a medio

hoy mismo hoy mismo lo que quieren es una reunión con carácter urgente y yo creo que eso

hemos llegado a una enmienda de transacción entre todos donde décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco primero a que junto con la diputación foral de álava y el ministerio de agricultura pesca y alimentación

del acuerdo marco interprofesional del dos mil quince dos mil veinte que se firmó entre las organizaciones agrarias y azucarera y que se establezcan los medios necesarios

marco interprofesional estableciéndose mecanismos sancionadores en caso de incumplimientos unilaterales que les inhabiliten para recibir cualquier tipo de ayuda o subvención también décimos en la enmienda de transacción que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a continuar el trabajo de negociación directa con la azucarera con el objetivo de lograr el mantenimiento de la actividad en las instalaciones de miranda durante las próximas campañas

en álava el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que junto con la diputación foral de álava y en el plazo de dos meses

alternativas para ello ambas instituciones conjuntamente con los agentes del sector impulsarán estudios y alternativas al sector remolachero

para impulsar la posible diversificación de cultivos priorizando su rentabilidad económica y social en estos trabajos están colaborando

en definitiva lo que estamos pidiendo aquí es que el estudio que nos dijo la señora consejera que ya se ha hecho

que desde los informes y estudios que tienen

y que junto con el sector se vea qué es lo que se puede aplicar

si se puede seguir produciendo remolacha que no sea azucarera que también se pueda destinar a otros objetivos también si se puede alternar con otro tipo de producciones y por lo tanto nosotros lo que

necesita que las administraciones trabajen codo con codo con el sector para darle una solución a esta situación crítica que

en álava muchas gracias a los grupos por la incorporación de algunas medidas a la enmienda de transacción y

la actividad de la producción ver si están consiguiendo avances en esa reestructuración que pedimos y esperemos que fructifique

bueno toca debatir en este segundo punto sobre la problemática del sector de la remolacha en araba pero no sería bueno

sin saber antes por qué tenemos un problema por qué hay un problema en araba y de dónde viene nos ha dicho la señora lópez de ocariz que el sector tiene una situación crítica por qué tiene una situación crítica qué ha hecho que este sector tenga una situación crítica pues muy fácil

eso es lo que ha traído a este sector a la ruina en menos de doce años además en menos de doce años

un mercado local pujante como era el sector de la remolacha porque si no hablamos de las causas y nos quedamos solamente en analizar las consecuencias

y solo hablamos de quién pierde son los agricultores y agricultoras que cultivan la remolacha cuando empecemos a hablar de las soluciones posiblemente estaremos hablando de parches y no de soluciones

es un mercado agrícola local el de la remolacha alavesa destruido por las normas del comercio internacional en beneficio de las multinacionales de la alimentación y al que ahora las instituciones locales

termine de desaparecer y hay que ayudarle por supuesto que hay que ayudarle nuestro grupo va a apoyar la enmienda de transacción

pero ninguna solución va a ser buena ya para este sector

hasta su desaparición nunca nunca va a volver a ser lo mismo el sector de la remolacha después de haber pasado por la trituradora del comercio mundial desde dos mil seis hasta dos mil dieciocho los números son de terror en europa han desaparecido ciento cuarenta mil productores y productoras de remolacha

de cultivo han desaparecido setenta y siete plantas azucareras han cerrado

abandonado la producción de cinco coma tres millónes de toneladas de azúcar europa ha pasado de ser el segundo exportador mundial a ser el segundo importador mundial y si no sabemos que es el libre comercio el que nos ha traído hasta aquí

adecuadas porque cuando la unión europea reforma el mercado de la remolacha a instancias de una sentencia de la unión de comercio mundial por una denuncia de brasil a australia y tailandia

es para hundir completamente el mercado y para poner este mercado en manos de las multinacionales cuando se abre el mercado del azúcar se sabe a ciencia cierta

el ochenta por ciento de la producción mundial que es de caña de azúcar va a inundar los mercados europeos se sabía perfectamente por qué nos lamentamos ahora

ella era la ministra de agricultura en pocos años en pocos años el parlamento europeo va a tener que votar el acuerdo que ya se está negociando con brasil y con mercosur el acuerdo de libre comercio

determinar de derribar los aranceles que tenemos ahora mismo sobre el azúcar qué van a votar los europarlamentarios que salgan de las elecciones de mayo

qué van a votar los europarlamentarios del partido popular y del partido socialista

van a votar a favor de la puntilla del sector de la remolacha alavesa

yo diría que sí y claro que tenemos

y es que los agricultores y agricultoras alavesas producen remolacha pero no la pueden transformar las plantas de transformación eran públicas eran públicas en españa quién las privatizó

la señora elena espinosa del partido socialista claro

barros vienen estos lodos claro que tenemos un problema ahora mismo tenemos una multinacional que controla el ochenta por ciento del mercado estatal de transformación qué hacemos cuando esa multinacional nos impone los precios que va a pagar por supuesto

están vendidos porque en dos mil veinte acaba el acuerdo en dos mil veintiuno y el siguiente va a ser con la mitad de precio y ahora le pedimos al gobierno vasco y a la diputación de álava que ayuden que empujen

qué vamos a votar con los siguientes acuerdos de libre comercio el problema de la remolacha ya lo tenemos

de la patata el de la cebada el del trigo

ha duplicado sus exportaciones de azúcar a españa las ha duplicado quién votó a favor del ceta claro es muy fácil es muy fácil

el problema lo tenemos lo tenemos cuando la clase política se centra

a un problema que la propia clase política ha creado a nivel europeo y nuestro grupo tiene que ser necesariamente crítico

pero ojo con las soluciones porque aquí viene la segunda parte estamos diciendo tenemos que mejorar la productividad

a toda costa es imposible las condiciones agroclimáticas de álava no dan para más ahora mismo la producción de

infinitamente más rentable en cualquier lugar del mundo para producir azúcar

en francia o en alemania con secano es más productiva que la alavesa con regadío qué hacemos en álava utilizar el regadío cada vez más aguas

y qué sucede que tenemos cada vez más hongos porque el suelo se mineraliza con los fertilizantes y los hongos campan a sus anchas y luego tenemos que utilizar productos fitosanitarios y entonces nos sale el precio de la tonelada a un precio que es totalmente incompetitivo

no vamos a poder competir nunca en productividad hemos destruido un mercado para nada para nada y en álava de dos mil seis a dos mil dieciséis queda un cuarto de los agricultores y agricultoras y ahora

es así las soluciones se plantean en la transacción que hemos firmado hay que diversificar los cultivos seguir cultivando remolacha azucarera para producir azúcar no

y por una vez por una vez hasta voy a estar de acuerdo con ella me gustaría que así fuera me gustaría que la remolacha azucarera tuviera futuro pero no lo tiene posiblemente

no se les puede seguir engañando hay que decirles de dónde les viene el problema y quién voto por que tuvieran este problema es muy fácil presentar aquí iniciativas en época preelectoral y a todas nos gusta a los agricultores y agricultoras que vamos a solucionar sus problemas pero posiblemente no va

medidas agroecológicas en lugar de intensificar la productividad en andalucía se está tratando de hacer rotación de cultivos con algodón y con tomate como digo

reduce la incidencia de los hongos y el menor regadío ayuda a tener un suelo menos mineralizado tenemos que buscar soluciones tenemos que buscar alternativas pero por favor no nos engañemos porque este sector ya lo hemos hundido por lo menos
aprendamos de esto para no hundir el siguiente gracias eskerrik asko becerra jauna

creo que estamos agotando un modelo y es más estamos dando unas esperanzas que no corresponden

aquí a la doce del mediodía va a ver una asamblea en arkaute del sector remolachero alavés

para qué bueno para recibir información para recibir asesoramiento que es lo que tiene que hacer efectivamente bien pero les estamos engañando siento decirlo

les vamos a decir cómo está la situación actual de la azucarera les vamos a contar todo eso como si no pasara nada como si la vida

se nos olvidara que la empresa ha roto el acuerdo marco interprofesional aquel que firmo en dos mil catorce aquel que nos llevaba hasta el dos mil veinte que de lo malo malo garantizaba unas condiciones así que en la asamblea que va a empezar a las doce del mediodía pues pocas novedades van a tener más allá de seguir empujándoles a sembrar remolacha a volver a hacer como hasta ahora sin saber muy bien que va a pasar después

yo no lo diría así yo creo que estamos agotándolo no solamente a este cultivo también a este modelo yo diría que estamos ante una reconversión rural no quisiera decir una reconversión remolachera solo es una reconversión rural

porque las amenazas vienen de fuera vienen de quienes deberían estar ayudando a que esto se mantenga que hoy estemos hablando de que la azucarera ha roto un acuerdo me parece absolutamente vergonzoso cuando es la industria cuando es la que tendría que empujar para que esto se mantuviese cuando es la que realmente saca beneficio de todo esto voy a hacer una predicción espero de verdad equivocarme

porque creo que estamos muchísimo más cerca de eso y porque además ya lo he dicho no debemos engañar a nadie la azucarera de miranda va a tardar muy pocos años en cerrar y eso el sector se lo está

pero nadie quiere mirar para adelante nadie quiere hacerle frente por qué la azucarera no está molturando

que son suficientes para ser rentables no lo está haciendo aquí tengo un artículo de ayer mismo que decía que ha bajado

al límite que le corresponde al límite que tienen para ser rentable

remolacha para mí ya está bien ya está bien

pues las ayudas agroambientales que así el título queda perfecto son súper verdes son absolutamente sostenibles como nos gusta decir ahora

tiene una duración concreta cinco años qué pasa que llevamos cuatro años con el sector metido en esas ayudas agroambientales qué pasa que esas ayudas agroambientales le obligan a seguir produciendo remolacha cinco años y estamos en el último

porque no ha cumplido con el pacto yo si soy sector vuelvo a sembrar remolacha el próximo año y ya veré si me la compran si no me la compran si me la pagan si me la dejan de pagar pero yo lo hago

desde luego no sé si corresponde a esta cámara pero sí que entiendo que a todos los

remolachero igual primario que la sociedad incluso o sea que todos los agentes que están ayuntamientos cuadrillas hay que hacer una apuesta esa apuesta cuál es más de lo mismo

mi compañero becerra hay que salvar al sector y décimos salvar

décimos que sigan en la uvi pero que no se mueran del todo no vaya a ser que luego como gobierno no hayamos conseguido mantener este sector tan bonito

las tierras como las conocemos decía usted que acaba de desaparecer un sector a toda velocidad no no es del todo cierto porque las fincas las piezas la tierra está ahí las piezas están labradas se están produciendo

decía es verdad que han ido cayendo los sectores cayendo del todo del todo no es verdad pero qué fue de las patateras

qué fue del vacuno de leche no sé si me equivoco mucho pero andaremos rondando las cuarenta cincuenta explotaciones que realmente están produciendo en una fórmula qué es de aquello que se hacía para producir alimentos

estamos teniendo un problema este modelo se está agotando y ahora es el momento de hacer la apuesta

porque estas apuestas estratégicas las hacemos yo creo que cada vez que pasamos por esta tribuna

y hasta cuándo seguimos haciendo apuestas estratégicas hasta que cierre hasta cuándo efectivamente el objetivo de la transacción es común pero yo voy a hacer una pregunta hoy

rompe el acuerdo marco interprofesional bien y de repente dice que va a bajar el veinte por ciento del precio para la siguiente campaña bien todo el mundo lo asume

qué hubiese pasado si un remolachero qué hubiese pasado si un colectivo de la remolacha dice que no cumple acuerdo que no siembra este año qué hubiese pasado hubiesemos venido aquí a defender al sector

tengo dudas la empresa es la que está gestionando todo esto y la empresa no lo está cumpliendo porque tiene una súper suerte que es que no le vamos a sancionar que nadie le va a sancionar que aunque lleguemos al arbitraje por ahí por mayo

se va a seguir saliendo con la suya ponía aquí en otro artículo también de estos días del veintiocho de enero el acuerdo marco de la remolacha corre peligro

azucarera lo iba a cerrar lo iba a romper y sabía que encima iba a salir ganando así que

directamente entonces qué estamos aquí mirando las causas mirando el fracaso del modelo no vamos a poner las pautas para seguir adelante desde euskal herria bildu lo tenemos yo creo que siempre hemos tenido claro hay que hacer transiciones

dé servicio de respuesta igual no para todos efectivamente pero si nos vale en eso estamos

entendemos que puede ser la fórmula que nos la tenemos que creer de nada nos sirve hacer grandes declaraciones de intenciones

tiene un montón de activos para poder hacer una estrategia agroalimentaria efectiva real dando alternativas a este sector

por el barranco hay que intentar darles soluciones y nosotros en ese sentido vamos a estar ahí voy pasando hojas

no se nos olvide que estamos con la mejora de regadíos alaveses que estamos con un embalse en barrón

a mí me pone los pelos de punta porque igual vamos a seguir haciendo

un proyecto de mejora de regadío efectivamente el regadío tendrá que ser necesario pero vamos hacia atrás vamos a ver para qué vamos a ver para qué si nos hace un embalse nuevo si no nos hace falta si queremos diversificar los cultivos si queremos diversificar y si queremos mantener los pueblos vivos no se nos olvide porque cada vez hay más agricultores que ni siquiera ya viven

voy a ir acabando aquí la empresa siempre gana y sobre todo ahora voy a hablar de las ayudas si la empresa rompía este acuerdo si la empresa

al rescate del sector ese rescate supone que el dinero va a pasar por encima de todo el sector y va a llegar directamente

corrientes de los agricultores alaveses y remolacheros se van a quedar exactamente igual de mal porque todo el dinero público va a ir a la azucarera estamos financiando desde las administraciones

que nos amenazan una vez detrás de otra así que siento ser tan pesimista espero cambiar durante el día y dar la vuelta pero me va a costar la verdad

desde luego estamos de acuerdo en obligar a cumplir el marco como defensa del sector no tenemos otro remedio también vamos a tomar medidas incluidas sanciones lo que tenga que ser para que la empresa cumpla

hay que buscar una estrategia a mí me gusta llamarla agroalimentaria porque entiendo que tiene que ir unida a la comida pero bueno tienen que estar todos los agentes unidos y coordinados

del sector primario lógico pero también del medio rural y que suponga una garantía de rentabilidad social ecológica y económica para el sector

presidenta señorías seguramente si no se hubiera vulnerado unilateralmente el acuerdo marco interprofesional no estaríamos hablando de la remolacha por eso es acertada la iniciativa de la señora lópez de ocariz porque

recomponer ese acuerdo tratar de influir políticamente para que eso se consiga y a la vez sabiendo que es un sector

mirar un poquito más allá y por supuesto de momento

defender el que la planta transformadora a la que los productores alaveses llegan con sus productos siga existiendo y también

que permitan que aquellos productos

dificultades a la hora de competir puedan ser orientados hacia otras producciones que puedan tener más rentabilidad yo creo que

y precisamente esa es la enmienda por unanimidad que se ha acordado entre los cincos grupos de esta cámara por lo tanto creo que más allá de los discursos el fondo de lo que se trae aquí y en el resultado de lo que se trae aquí

la lógica y la razonable tenemos un problema un problema de bajada de precio unilateral de una parte de ese acuerdo marco interprofesional y por lo tanto

que las instituciones entremos a compartir el problema

y así lo han hecho todas las instituciones vascas hoy lo está haciendo el parlamento y así también se viene trabajando desde el gobierno vasco intentando que el acuerdo se recomponga

esta es la parte que me parece que es la parte sustancial

a partir de ahí se pueden hacer muchas reflexiones se puede hacer la reflexión de si el comercio tiene que tener fronteras o no yo creo que actualmente hay algunas experiencias muy notables y muy importantes en el mundo

se generan problemas económicos y de crisis económica importantísima que va en cadena y que va golpeando de forma

un asunto que también me parece quizás en otro marco se puede tratar con profundidad si el comercio del mundo en el que vivimos de ese mundo de la globalización es un comercio que tiene que tener fronteras

y cada cual dónde las establece y para qué yo creo que hay muchas experiencias de países estrangulados económicamente aun siendo ricos instalados en la pobreza aun siendo ricos por establecer fronteras políticas y yo creo que con esto hay que tener bastante cuidado

el sector agrícola como otros sectores pero que el sector agrícola necesita

me parece absolutamente impepinable pero qué es una democratización en la distribución

es poner fronteras o es ir a una participación integral

no solamente en producir sino también en transformar y también en distribuir hay experiencias dentro de la unión europea muy importantes hay regiones europeas súper potentes en esta materia que no solamente producen sino que transforman

distribuyen que tienen hasta finalmente el punto de venta que tienen

de financiación y que les permite sacar una rentabilidad importante a sus productos y garantizar la venta de sus productos y poder atender razonablemente a los costes mediante la intervención directa de los propios productores en esos sistemas de economía social en el precio

camino que hay que explorar un camino que da vértigo que da miedo que aquí en ese sentido tenemos un retraso en relación

esa política de producción y de comercio que hay en otros lugares pero me parece que ese es un camino

con más intensidad con más decisión con mayor agrupación de productores en todos los sectores para poder hacer ese itinerario integral y para poder beneficiarse de la rentabilidad de sus propios productos y bueno yo creo que

el camino pero quizás esta es una parte reflexiva y de análisis

exactamente para la iniciativa que nos había traído la señora lópez de ocariz que es cómo recuperar en el corto plazo que es lo único que se puede hacer porque de aquí a los dos tres próximos meses no se va a poder transformar el campo no habrá productos alternativos no habrá una transformación de otra manera no habrá una venta de producto de otra manera

al tiempo en el que se está decidiendo cuál es la rentabilidad de este producto para comprar semilla y para poder volver a sembrar es la recuperación del precio por lo tanto yo creo que

en centrar en lo que es la disposición de la enmienda transaccional en esa recuperación del precio y en pedir a todo el mundo que se implique

interprofesional se cumpla el acuerdo como ya se ha mencionado tiene una mesa de seguimiento tiene también

a nosotros obviamente pero bueno tiene ese sistema y

y que la influencia política y la adhesión política a los productores para simplemente recuperar lo que es justo que es el cumplimiento de ese acuerdo marco

de ese mes de mayo nada más eskerrik asko prieto jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi pues menos mal que habíamos firmado por unanimidad porque si no

y la verdad es que no es la primera vez ni seguramente la última que hablemos de remolacha en este parlamento lo mismo en comisión que en pleno y aunque

para mí y para nuestro grupo es tan relevante como hablar de la naval la remolacha es un cultivo que desde hace muchos años funciona correctamente en araba

que históricamente establece contratos con los agricultores y por tanto garantiza unos precios que mejor o peor

podían los agricultores alaveses mejorar más o menos la productividad de la remolacha

a ello habría que añadir que tanto el sector productor como el transformador ambos además muy estructurados

para de esa manera seguir mejorando la rentabilidad del cultivo no ha sido tampoco la perfección pero hay que reconocer que dentro del sector agrario ha sido el más estructurado y el que mejor aseguraba las rentas de modo que se garantizó durante muchos años

las cifras no las voy a volver a repetir pues se han dicho por activa y por pasiva pero sí voy a remarcar que pese a todo

este abandono paulatino derivado tanto porque algunos

como porque la rentabilidad ha descendido

se está acentuando por la decisión de la ue de eliminar cuotas desde dos mil diecisiete provocando un terremoto sectorial y aquí voy hacer un inciso el problema es que la ue toma la decisión de unas cuotas no el comercio internacional señor becerra no se me invente

como si canadá fuera el súper productor de remolacha azucarera del mundo canadá tiene exactamente ha bajado un diez por ciento en tres años tiene siete mil seiscientos hectáreas de remolacha y solo araba tiene

usted cree que canadá va a romper el mercado de la producción de remolacha europea porque exporte de siete mil seiscientos hectáreas oiga no venga a inventarse cosas es más

ha supuesto que la unión europea ha exportado a alemania a canadá un ocho por ciento más de alimentos europa

porque tenemos sobreproducción porque se ha eliminado la cuota no es un problema del acuerdo ceta ni del ttip que en eso

están de acuerdo en que no es bueno en eso miren mírenselo porque están de acuerdo los dos pero no tiene nada que ver el acuerdo ceta canadá no hace remolacha para nada ni para ello si fuera jarabe de arce pues hombre podríamos pensar que ellos van a romper el mercado mundial de jarabe de arce pero de remolacha azucarera para nada mire

por la quitada de cuotas han producido mucho más alemania y francia francia solo un treinta por ciento y claro no hay que ser doctor en matemáticas

que en el mismo mercado si uno sube la producción el precio baja

y el precio ha bajado un treinta y seis por ciento eso es lo que está ocurriendo

no el mercado internacional y en este contexto es cuando la azucarera decide bajar el precio que nosotros discrepamos radicalmente y queremos que se revierta y por eso lo pactamos en la transacción si a todo ello le añadimos que el azar en este caso la meteorología de este último año ha sido de los peores

de los últimos veinte años y por tanto tenemos la tormenta perfecta para que un sector asentado históricamente en araba apunte a una crisis crisis de muchas personas

y del mundo rural añadiéndosele además a esto el potencial abandono de tierras agrarias que eso es lo que nos debe de preocupar en todo este movimiento de deterioro sectorial tanto la diputación foral de álava como el gobierno vasco por cierto no les han dejado solos en ningún momento al sector remolachero

las dos instituciones acordaron un plan sectorial del dos mil siete al dos mil diez

y aumentar la competitividad a partir de mejoras tecnológicas

adoptando medidas previstas en la producción sostenible en la producción integrada se mejoró tecnológica y ambientalmente y en dos mil diez se aprobó un segundo plan de apoyo

seis millónes de euros y la superficie aunque subió ligeramente la productividad sí subió más de un quince por ciento acabados los planes sectoriales se autoriza por la ue

que son las ayudas autorizadas a sectores en crisis por un máximo de tres años y paralelamente

que supone disminuir la productividad bajando los riegos bajando el abonado y compensarle la falta de producción con dinero

es decir que tampoco se sigue aumentando la producción el abonado el regadío todo lo contrario las ayudas agroambientales son todo lo contrario

se inventa una cosa y como nadie le lleve la contraria ahí queda fijado y yo creo que ya está bien

colaboran con ellos y no les han dejado en ningún momento solos otra cosa es que a pesar de todo se sigue abandonando ya digo hay un envejecimiento de la población agraria importante y además empiezan a encontrar otros productos agrarios que

para sacar la misma rentabilidad o superior y a partir de ahí ya es donde tenemos que optar por diferentes caminos una vez hecho el diagnóstico de lo que está pasando siendo uno que no necesariamente el más lógico el de darle continuidad al cultivo para lo que hacen falta dos cuestiones básicas

y la continuidad de contratos con precios garantizados de ahí las dos primeras propuestas de la enmienda el problema de la remolacha de hoy es el derivado de una manera de hacer de la unión europea en la que nosotros nuestro grupo está totalmente en desacuerdo mucho más lógico sería volver al esquema de cuotas que tanto ha equilibrado en general muchos cultivos en la unión europea pero independientemente de que lo demandamos no vamos a volvernos locos esperando esa vuelta de cuotas porque ante la situación actual y previsible de futuro

hay que esperar un tiempo a que se equilibre el sistema productivo europeo aunque yo creo que lo más probable es que los países del norte francia y alemania sigan incrementando la producción de remolacha azucarera porque aunque son menos productivas son mucho más rentables no porque echen menos abono no porque por una cosa tan sencilla como la meteorología allá llueve mucho más y no necesitan del regadío y el regadío el coste del regadío

provoca que aquí las rentabilidades sean menores aunque las productividades son mayores ellos son mucho más eficientes que nosotros y ya sobre la continuidad de la azucarera de miranda muy importante sería un aspecto esencial es una decisión que es que resulta que además de estar ubicada en otra comunidad autónoma depende de una multinacional ubicada en gran bretaña aunque podemos debatir si el gobierno vasco también tiene que comprar las acciones

y cogiendo empresas por todas partes si a ello le añadimos que el azúcar producto obtenido en este cultivo está cada vez más acusado de todo tipo de tropelías sanitarias por las administraciones de salud y pueden ustedes bajar y echarle la culpa también al señor darpón de que baje el precio de la remolacha azucarera porque

también es relevante pero resulta que eso también es importante para que baje el mercado del azúcar y por tanto bajen los precios del azúcar la culpa

entonces habrá que abrirse a otras posibilidades habrá que ver el potencial de la superficie hoy dedicada a remolacha para otro tipo de cultivos porque

para bien o para mal según se mire pero evoluciona y es posible mirar más allá de la remolacha azucarera y es que cuando hablamos de sector agrario

lo más urgente es hablar de la prioridad que supone mantener en activo la superficie cultivable fundamentalmente para mantener una actividad económica y por tanto población

polarizado hacia las urbes y para cohesionar el territorio debemos mantener actividad económica en el mundo rural siendo la más lógica y razonable la agricultura

hay capacidad de producir alimentos y cada vez hay menos personas es imprescindible darle sentido al campo a través de la productividad agraria y así fijar personas en el territorio

y después independientemente de que se pueda seguir cultivando remolacha de un modo razonable es necesario trabajar para que las alternativas a este cultivo se instalen en una comarca que lo necesita

y la alimentación hoy por hoy pocas oportunidades de generar desarrollo económico tiene de ahí en conclusión que apelemos al gobierno y a la diputación de araba para que conjuntamente con el propio sector trabajen por una recuperación de la capacidad de producción rentable de las explotaciones

lópez de ocariz andrea sí gracias señora presidenta si me lo permite desde el escaño
pues para agradecer a todos los grupos aparte de

modelos mayor o menor definidos y que se expongan no está mal pero lo importante hoy

el acuerdo que como ha dicho el señor tellería lo que propicia es que estemos

lo antes posible que trabajemos a medio y largo plazo para ver cómo reestructuramos el sector y algo que lo he dicho antes y que me gustaría recalcarlo es

para como digo generar la certidumbre necesaria para que

más aceptables que la situación que tienen hasta ahora nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea beste norbaitek hitz egin nahi du elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

por supuesto que este acuerdo es importante es un acuerdo al que ya se llegó en las juntas de álava pero no es suficiente no es suficiente por mucho que acordemos aquí el mal ya está hecho el mal ya está hecho me llama la atención

cuando posiblemente este es el único discurso en lo que llevo de legislatura que no me he metido con el gobierno vasco que no me he metido con el gobierno vasco

que las instituciones vascas están haciendo lo que pueden pero no va a ser suficiente

pero no ha sido causado aquí ni se puede resolver aquí y es un drama

porque eso imposibilita a las instituciones vascas para dar una respuesta satisfactoria

siempre será poco y siempre estará mal he criticado en efecto que las ayudas que haya dado la diputación en su momento fueran para mejorar la productividad tengo aquí una noticia

a mejorar la competitividad en la producción de la remolacha aplicando el plan sectorial de la remolacha con las medidas técnicas incluidas en el plan dice aquí señor tellería

ante una posible liberalización en la contratación de remolacha y yo lo que he dicho es que por mucho que intentemos mejorar la productividad álava nunca va a poder competir en productividad ni con alemania ni con francia ni mucho menos con los países productores de caña

está nuestro problema no es canadá el problema el problema se llama brasil

organización mundial del comercio fue la perdida la derrota en esa demanda lo que provocó a la unión europea

pero ahora no estamos obligados a firmar un nuevo acuerdo de libre comercio con mercosur ni con brasil yo les vuelvo a emplazar

a que digan en los próximos cinco años si ese acuerdo con mercosur llega al parlamento europeo qué van a votar qué van a votar

hay se juegan las ultimas opciones de la remolacha azucarera alavesa y además

yo no sé puede que a algunos les extrañe que yo esté en contra del libre mercado yo estoy a favor de los mercados justos

ni aquí ni allí lo único que garantiza es que ganen las multinacionales ese es nuestro problema

encima se blindan esas multinacionales con los que eufemísticamente se llaman acuerdos de arbitraje

son antidemocráticos porque soslayan el sistema judicial a mí me llama la atención que si ahora mismo

incumple los acuerdos los agricultores no puedan ir a juicio tengan que ir a un sistema

es antidemocrático antidemocrático y tengo que coincidir con la señora

la empresa siempre gana la multinacional siempre gana

que quiere reducir el veinticinco por ciento de lo que le pagan los agricultores y agricultoras alavesas de remolacha ganó el año pasado uno coma tres millónes de libras antes de impuestos antes de impuestos no pierde dinero sigue ganando

es la dueña por cierto y esto lo digo para los amantes del consumo responsable de primark

lo digo porque no vaya a ser que hagamos una manifestación en favor del sector remolachero en madrid

de la que la multinacional utiliza para explotar en otros países a gente que produce esa ropa nada más muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko solo un minuto porque estoy más incómodo desde allá me cuesta más y me siento más cómodo apoyándome aquí sin más mire

es verdad pero se ha metido con los grupos parlamentarios que suscribimos y apoyamos

en un debate parlamentario y yo le he venido a demostrar y usted cuando lea las actas verá que nos ha contado

de la inundación de remolacha de europa que canadá textualmente lo ha dicho duplicó su exportación

a dos remolachas esa puede ser porque no producen ni para mi comunidad de vecinos de verdad es que que tienen solo el triple de superficie que todo araba

con cosas a partir de ahí hay que trabajar hombre ya digo que por lo menos tenemos un acuerdo unánime que es lo que queda y el debate bueno pues pasará

la productividad ha aumentado jamás seremos capaces de tener no la productividad tenemos mucha más productividad que francia muchísima más somos menos rentables es que

producimos por hectárea mucha más remolacha que francia pero francia no tiene regadío tiene agua que le cae y eso

porque no les cuesta mucho cuando digamos ha quitado las cuotas europa ese es el problema y a partir de ese problemas diagnosticado así

la culpa la tenemos en europa habrá que tomar decisiones y la decisión es hablar con los agricultores y decirles a lo mejor la remolacha azucarera no es lo mejor

y además si lo hacemos unido a un proyecto de transformación mejor que mejor que es lo que tiene que ser porque la remolacha ha funcionado bien porque tenía una empresa de transformación

lo importante es seguir dándole uso al suelo agrario que no lo perdamos

a poder ser joven en los municipios porque si no este país está abocado

y perder el territorio y perder la capacidad la posibilidad estratégica de seguir produciendo alimentos y tendremos mucha biodiversidad
pero nos faltará una especie la homo sapiens muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

isiltasuna mesedez es verdad que en el este parlamento y en mi grupo

hablar de la remolacha a hablar de eventos deportivos a hablar del fútbol hace quince días presentamos una interpelación relacionada con un evento deportivo a celebrar en san mamés

dije en ese momento y que quiero repetir ahora sin perjuicio de que haya otros campos en euskadi

es un campo del que tenemos que estar orgullosos todos los vizcaínos y todos los vascos

la verdad es que después de lo que había dicho

se preguntó por este asunto yo pensaba que realmente cuando presenté la interpelación y por lo que me iba a contestar

porque allí se dijo en juntas generales de bizkaia se dijo que habíamos llegado tarde pues yo pensaba aquí se me iba a dar información de cómo estaba la propuesta que nosotros hacíamos

su devenir y pensaba que con las explicaciones que me iba a dar el consejero no iba a ser necesaria presentar la moción porque realmente la propuesta que hoy traemos aquí

nos contó que él no sabía nada es más su conocimiento de lo que yo le estaba planteando lo fundó en dos notas de prensa y terminó su turno de palabra señalando y cito literalmente deduzco

no contamos con ninguna iniciativa la verdad es que nuestro grupo no se puede creer yo no me puedo creer que si hubiera alguna iniciativa al respecto ya encarrilada el gobierno vasco no lo conociera

y también se preguntó en este caso porque ya era una moción a los grupos que apoyan al gobierno

cómo se había formulado la petición qué competición se había solicitado concretamente si había algún documento pues no se contestó nada por lo tanto

que hoy presentamos está justificada porque además en su momento

se llamó a esta iniciativa como una iniciativa aspiracional con lo cual parece que en firme no hay nada

es cierto si uno va a los estatutos que la gestión y la explotación corresponde al athletic pero también es cierto que existe la obligación de ceder el campo a cada uno de sus socios para la realización de eventos en las circunstancias y condiciones que aparecen en el anexo cuatro

convenio que se firmó en su día por lo tanto como digo el gobierno vasco tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar para que un evento deportivo como el que proponemos venga a san mamés en definitiva venga a bilbao a bizkaia y a euskadi como dije

en la interpelación la iniciativa si se ve desde un punto de vista estrictamente deportivo como un evento deportivo que puede ser utilizado

intereses políticos o partidistas creo que es una iniciativa con la que se puede estar de acuerdo porque como digo no tiene ninguna connotación política porque estarán de acuerdo conmigo que el fútbol te puede gustar o no gustar pero desde luego el gusto por el fútbol al que le gusta es absolutamente transversal

les gusta el fútbol y los vemos en el fútbol y apoyan el fútbol es una iniciativa concreta sí

que no entra en contradicción con lo que se ha propuesto por otros grupos de la posibilidad de organizar o que se celebren otro tipo de eventos deportivos culturales que se traigan a

sin embargo lo que proponíamos es bien concreto y bien sencillo y es que

de fútbol y a parte de esa connotación deportiva que como digo a mí sí me gusta el fútbol pero no se trata de los gustos personales

que puede influir de manera favorable en todos los vascos les guste o no les guste

en el país vasco los beneficios económicos han sido claros en la interpelación di los datos de las finales de rugby celebradas en bilbao o de la etapa de la vuelta ciclista a españa el impacto económico directo

aquí que fueron a nuestros restaurantes que cogieron nuestros transportes y el indirecto también en forma de personas de países que vieron las retransmisiones por televisión de la publicidad que se consiguió de la publicidad que esos visitantes van a hacer

se valoró como destino turístico o la posibilidad de que ellos mismos repitan la visita también la población de bilbao consideró que el evento había tenido un impacto positivo los datos de otras ciudades que han organizado o que van a organizar

tendrá una repercusión prevista en términos económicos y de imagen que rondará los cuarenta o cincuenta millónes de euros se estima que

de cuatro días más todas las personas que ocupen la fan zone el día del propio partido por lo tanto como le decía en la interpelación al señor consejero los beneficios económicos de publicidad de imagen internacional que suponen para bilbao

euskadi además de los recursos económicos

somos un territorio muy pequeño en el que si alguien va a ver un partido a bilbao

a vitoria sin ninguna duda y el señor consejero me hablaba de otro tipo de eventos y me hablaba del campeonato del mundo de sokatira que se celebrará en getxo

me parece estupendo o no deportivo como otros que ha habido en bilbao pero hombre no me negarán que el fútbol tiene

por ejemplo que la sokatira como dije en la interpelación existen tres competiciones que se pueden traer sobre la champions la final de la champions

y lo dije allí y lo vuelvo a reiterar hoy a pesar de que esta parlamentaria ha intentando mandándole

se determinará no sabemos en conversaciones privadas absolutamente extraoficiales

no podría san mamés albergarla pero bueno en cualquier caso existen otras dos competiciones importantes como son

que es un evento de primer nivel que desde luego se ajusta perfectamente a

la supercopa de europa que en este momento tiene mucha más relevancia y mucho más interés del que ha tenido en épocas anteriores por lo tanto estamos hablando de eventos de primer nivel que como decía antes el impacto económico tanto directo como indirecto que a veces es difícil de cuantificar porque es intangible es desde luego indudable

está en la línea de lo que las instituciones vascas vienen apoyando y en la línea de lo que muchos partidos políticos venimos demandando y apoyando

lo decía antes y lo quiero reiterar a mí que me gusta el fútbol es verdad que a veces me molesta que

del fútbol y que es necesario traer otro tipo de eventos deportivos pero también estarán conmigo que apostar por un evento futbolístico de estas características es apostar sobre seguro es apostar sobre seguro porque no hay más que ver los antecedentes que hay en otras ciudades para saber

el fútbol y las personas como digo que pueden venir a bilbao a euskadi que pueden comer en nuestros restaurantes que pueden estar en nuestros hoteles que pueden utilizar nuestros transportes que pueden hacer gasto en nuestros comercios creo que eso absolutamente innegable que es un reto desde luego que es un reto es un reto organizativo de que somos capaces de dar la talla en organizar un evento de estas

desde luego es un reto también para la seguridad indudablemente hace no mucho tiempo salieron dos sindicatos diciendo esan y erne concretamente

precisamente este tipo de eventos no era suficiente pero yo creo que es cuestión de que estamos hablando del año que viene

bastante más adelante es cuestión de atender esas demandas que hacen

porque creo que nuestra policía está perfectamente capacitada para actuar en eventos de estas características siempre y cuando como digo bien organizada como décimos es un reto para todas nuestras infraestructuras pero además de un reto como decía es una oportunidad y creo que al reto

en euskadi y desde luego la oportunidad no la podemos perder y como decía porque además creemos que tenemos

una ciudad para enseñar un territorio para enseñar y una euskadi para enseñar creo que no podemos perder la oportunidad precisamente de

cuando tenemos un estadio de cinco estrellas aunque esté catalogado de cuatro por parte de la uefa

una ciudad de cinco estrellas un territorio histórico de cinco estrellas que perdamos la oportunidad de poder enseñárselo

hacer la solicitud porque no nos olvidemos de los plazos esto no se consigue de un día

a finales del año pasado ya presentó la solicitud por qué porque la resolución la votación se va a hacer en junio de este año en junio de dos mil diecinueve

a partir del dos mil veintiuno dos mil veintidós creo que es necesario que esa decisión se tome que como digo es verdad que la solicitud la tiene que hacer el athletic pero es verdad que el gobierno vasco la diputación y el ayuntamiento tiene mucho que decir es una iniciativa

no podemos ir allí pero se ha presentado en el ayuntamiento se ha presentado en juntas generales y se presenta

tener ese impulso para que ese evento deportivo

a bilbao y yo creo que como decía si se dejan a un lado intereses políticos partidistas y se ve únicamente el deportivo y el interés general de la ciudadanía

que puede ser apoyada hemos llegado a una enmienda de transacción yo creo que en esa enmienda se recogen dos cuestiones que son absolutamente compatibles una es este como decía este evento específico esta petición específica para la que nosotros pedíamos apoyo pero sin renunciar evidentemente

de la comunidad autónoma del país vasco de las diputaciones de los ayuntamientos pues se sigan

de traer acontecimientos económicos culturales recreativos y deportivos que redunden en beneficio de nuestra comunidad y sus habitantes porque ese ha sido el objetivo de nuestra petición más allá de los gustos personales de los gustos deportivos

de que a la ciudadanía en general le pueda gustar porque tiene una relevancia económica un interés económico y creemos que puede ser una buena oportunidad para euskadi espero

egun on denoi hoy nos toca debatir sobre una moción presentada por la señora llanos que nos vuelve a insistir

en esta cámara y en otras instituciones pero de forma

un partido oficial de futbol masculino y de carácter internacional en el estadio de san mamés en este caso concreto

de clubs de futbol de inicio cabe señalar señora llanos que su propuesta demuestra claramente

de este país y nos trae una iniciativa de tanto calado social tan inclusiva

como es que san mamés un recinto financiado con dinero público acoja la celebración

para beneficio económico de unos pocos las calles y las plazas de euskadi

que reivindican lo que usted nos propone y superan con creces a las de pensionistas trabajadoras que luchan por mejorar sus condiciones laborales como las de la naval

padres y madres que piden una educación de calidad para sus hijas y otros muchos colectivos

que estamos en precampaña y son ustedes expertas en mezclar sentimientos y política para confundir a la ciudadanía y que no se hable de los derechos

por qué su moción nos parece a mí y a elkarrekin podemos que solo busca la foto y el titular

de un comentario de cuñados en comidas familiares que parte fundamental del trabajo de una institución para empezar usted solicita que san mamés sea sede

masculino masculino porque ustedes en ningún caso se refieren y se preocupan por el deporte femenino y más específicamente por el futbol femenino

y nos preocupa que se hable de visibilidad que se nos llene la boca con la promoción del deporte femenino pero a la hora de la verdad se obvie a la mitad de la sociedad que practica deporte en este caso a las mujeres y más cuando hace veinte días

acudieron a san mamés para presenciar la semifinal del campeonato de la copa de la reina

convirtiendo este encuentro en el de mayor número de asistentes registrado en un partido de futbol femenino en españa

de impulsar el futbol femenino que se encuentra en un momento de evidente expansión y crecimiento y más en euskadi cabe recordar además que el otro semifinalista y clasificado ya para la final de la copa de la reina es la real sociedad no se preocupe señora romero yo se lo digo y disputará además la final prefieren ustedes plegarse a los intereses económicos de las federaciones internacionales y grandes empresas que manejan

sigamos usted en su intervención ha defendido que este tipo de eventos

y a nosotras nos surgen varias dudas al respecto porque en otras experiencias similares de macroeventos deportivos que se han celebrado o que se van a celebrar

aquí en gasteiz de baloncesto se está demostrando que se explota a las trabajadoras solicitando voluntarias

y desde las instituciones deberíamos trabajar para que se garanticen condiciones laborales dignas y que el empleo que se genere no sea en precario además

durante estos días porque quien paga las consecuencias del incremento de precios en hoteles restaurantes y comercios son las vecinas de las ciudades donde se realiza el evento

preguntémonos señora llanos quién se enriquece y qué coste real supone un evento así para la ciudadanía además para nosotras para elkarrekin podemos

de la oferta de eventos en todo el territorio y que no recaigan y se concentren siempre en los mismos puntos no caigamos en el bilbocentrismo

anunció la inversión de cincuenta y cinco millónes de euros para colaborar en la financiación del nuevo estadio

o para grandes conciertos sino todos los días del año

con el dinero de todas debe acoger no solo partidos de futbol sino también

donde desarrollar actividades que fomenten los valores deportivos y el ejercicio de otras modalidades existen otras modalidades aparte del futbol aunque parezca que siempre es el único y el que está en todos los medios menos mediáticas cuyas instalaciones municipales deportivas no están en las mejores condiciones

para utilizarlo todas asimismo públicamente se explicó que el ejecutivo autonómico había accedido

de la ciudad porque se iba a disponer de varios miles de metros cuadrados para poner en marcha espacios deportivos de uso público entre ellos un módulo de atletismo a día de hoy el actual gobierno vasco no se plantea abordar estos proyectos de manera inmediata

en varias ocasiones tampoco tenemos noticias en el ayuntamiento de bilbao de que se prevea construir un polideportivo municipal con piscina en el espacio que le adjudico la sociedad

y dar servicio al barrio de basurto no podemos reclamar inversiones en grandes instalaciones donde celebrar grandes eventos y acontecimientos de gran magnitud

y que esos supuestos impactos económicos de los que usted me habla para justificar estos eventos se repartan de manera poco equitativa y nunca lleguen a los barrios tenemos que poner el foco también en los equipamientos municipales

para que todas las personas puedan realizar con normalidad la actividad física que deseen fomentando y dotando de recursos al deporte de base no

en el deporte en euskadi como ya saben nosotras hemos presentado una enmienda a la totalidad en la que solicitamos a que el gobierno vasco como socio de la sociedad

en su consejo de administración un proceso participativo para que la ciudadanía pueda decidir

y de ocio desea para este equipamiento deportivo incluidos los partidos de cualquier disciplina tanto de equipos femeninos como de equipos masculinos

donde nosotras hemos querido poner el acento como sabemos

cuenta con la participación de las instituciones públicas vascas ya que contó y cuenta con la financiación de todas las vascas nos guste el futbol más o menos seamos

no es por ello por lo que entendemos que se hace necesario abrir un debate

muy limitados en la actualidad a las decisiones de unos pocos y siempre

por qué no abrir un debate participativo para decidir usos alternativos y sociales

defender un uso limitado de una infraestructura pagada con dinero público así que invitamos al resto de grupos a sumarse a nuestra iniciativa más inclusiva que la que hoy nos trae la señora llanos

que sepa conciliar de forma adecuada las diversidades que hoy conviven en euskadi el trabajo a favor del deporte femenino las apuestas por los valores de solidaridad trabajo cooperativo y respeto que hunde sus raíces en la concepción del deporte de base y que tan esencial es para el crecimiento de una sociedad

cuantas ideas y sentimientos quepan en su seno en definitiva desde elkarrekin podemos

a la realización de este tipo de eventos por ello nos vamos a abstener si bien hemos querido señalar

así como tan necesaria reflexión al respecto

con sede en este caso en san mamés si los empleos que genera son de calidad y si toda la ciudadanía no solo una parte

más aun cuando la financiación corre a cargo de las instituciones públicas por ello defendemos una propuesta más participativa inclusiva diversa

podamos hacer uso de un espacio con tantas posibilidades como es san mamés con estos eventos no se sabe quién va a ganar

y asegurémonos de que nadie pierda eskerrik asko eskerrik asko

por lo que a este tema respecta y para que nadie se lleve a engaño es que las competiciones europeas de fútbol

pues también a ellas si es posible aunque tampoco es una excesiva novedad en dos mil veinte es decir el año que viene

glasgow san petersburgo ámsterdam múnich copenhague budapest bucarest y roma la villa de bilbao y el estadio de san mamés se constituirán en sede de la eurocopa de fútbol

se organizará entre ciudades pero no solo de fútbol viven las ciudades hay más eventos de todo tipo culturales deportivos económicos sociales sobre los que también hemos de poner el foco las finales de rugbi los partidos de competición

finales de otras competiciones deportivas tanto masculinas como femeninas la posibilidad de traer en el futuro equivalentes homólogos al festival de la mtv la vuelta ciclista

europeo de baloncesto a una ciudad por ejemplo donde el baloncesto es un referente como vitoria gasteiz

en fechas próximas sin olvidar los mundiales de pelota de sokatira que también que celebrará próximamente en getxo o por qué no

y por qué no si un día la gala de los oscar decide deslocalizarse de los ángeles pues yo propondría donostia

en eso que algunos llaman el marco incomparable amén de toda clase de ferias y congresos y conciertos que pudiéramos albergar azken finean

zuen interpelazioan esan zuen bezala apoyaremos cuantos eventos resultan de interés económico deportivo cultural y social para la promoción internacional de euskadi para beneficio de su actividad económica y para el disfrute de la ciudadanía

gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas yo creo que

planteada era una moción clara específica no tenía la más mínima duda para ser interpretada

porque es un campo que nos pertenece a todos en el espíritu y también porque todos y todas hemos

que también el parlamento vasco pueda interceder e impulsar aquellas cuestiones a través del gobierno vasco claro puedan ser organizadas en dicho estadio yo coincido no voy a repetirme

en los beneficios de un evento deportivo por supuesto también los culturales y

de ese beneficio económico directo y del indirecto que se produce por la circulación del dinero en la primera instancia depositaria además

de todo el país somos un país pequeño y viniendo a bilbao puedes pernoctar perfectamente

y todo puede ser enseñado por lo tanto insisto no hay ni un pero que poner el pero que poner únicamente es que se actúe con responsabilidad

actuar cuando se haga este evento si finalmente se realiza y es posible celebrar

de campeonatos de clubes europeos es que se responda desde el ámbito de seguridad y que se responda también desde otros ámbitos como ha dicho la señora

garcía en representación de podemos en relación a cómo se organizan y cómo se establecen

de un gran evento hay todo es compatible es verdad que se puede poner de hecho la aportación

también algo interesante el posibilitar un proceso participativo para este y para otros usos que se quieran destinar algo tendrán también

el propio consejo también podría tomar esta iniciativa si escucha el debate de poder instalar o empezar a promover ese proceso participativo insisto me parecía interesante con respecto a la iniciativa dicho esto no nos queda

y lo que haremos la próxima semana en el ayuntamiento de bilbao por eso junto esas dos instituciones está también el gobierno vasco y lo mismo pensábamos debía de pedírselo al gobierno vasco insisto porque además esto no es un beneficio que redunde solo en torno a un territorio

en beneficio de todo el país no me voy a alargar más si digo a

si la iniciativa era si queremos que se celebre queremos que se celebre por las razones

en cuanto a la segunda parte ahora transaccionada con el grupo nacionalistas vascos estamos de acuerdo es un principio de todo gobierno intentar traer todos los acontecimientos

que puedan a nuestro país y además que redunden en beneficio del mismo y de su ciudadanía por lo tanto no podemos estar en contra de un principio básico que sabemos que el gobierno vasco tiene obligación de hacer y hace además en todos los ámbitos que he citado creo que una vez

se ponga en marcha y que simplemente esta solicitud no debe quedarse solo los focos en los titulares y en las tribunas

una cosa es hacerlo y otra cosa es conseguirlo para eso creo que a lo mejor los intereses partidistas o políticos pueden no hacer muy viable o si los hay se hagan por detrás para ayudar y para

y hacerlo de manera privada para que ese objetivo se consiga es lo mismo que

en privado a la señora llanos no se trata de quién lo presenta ni de victorias o derrotas

el objetivo sino además de conseguirlo insisto no hay más razones es positivo es posible

citadas y es clarito entonces donde se pide a si estamos de acuerdo
pues votamos a y no décimos b para votar a gracias eskerrik asko romero anderea

yo creo que desde que se celebraron en el año mil novecientos noventa y dos las olimpiadas en barcelona y después la expo de sevilla y otro montón de cosas que se celebraron en el estado español

es algo que está en la boca de todo el mundo y este fenómeno no es extraño a las vascas no es extraño a los vascos porque en algunos

comunidades en concreto se le ha dotado de un carácter estratégico y es una forma que algunas instituciones piensan que hay para promocionar pues el país para promocionar las ciudades incluso para justificar inversiones

no había mucha actividad o donde solo hay una actividad concreta y en los últimos tiempos es verdad que esto ha sido para san mamés barria ha ido unida la actividad a este tipo de políticas

que igual a alguien seguramente a mi compañera la señora garcía le va parecer muy pomposa pero tengo que decir que

es el mejor campo del mundo y por qué es el mejor campo del mundo porque juega el mejor equipo del mundo que es el athletic de bilbao y esto lo tengo que dejar muy claro y creo que en esto habrá más compañeros y compañeras parlamentarios que estarán de acuerdo conmigo pero también tengo que decir que en ese campo que es el mejor del mundo

comparten propiedad y disfrute y también gestión instituciones diferentes

para evitar errores el que tiene la gestión la gestión en exclusiva de momento con lo cual

que son participativas donde tendrá que decidir qué cosas hace o qué cosas no hace

a tener en cuenta en la proposición porque las y los socios compromisarios del athletic también tenemos algo que decir en estas cuestiones no solamente

creo que se dice toda la verdad cuando se dice que san mamés barria solo se utiliza para el futbol porque eso no es así en san mamés barria en los últimos tiempos ha estado gure esku dago

ha habido más cosas y ahora se plantea que haya eventos de clubs por cierto yo salvo error u omisión en la iniciativa no he visto en absoluto que sean masculinos no pone la palabra masculino pero bueno igual me he equivocado si admitimos que el deporte es cultura y

tiene también un elemento económico es decir que hay ingresos y gastos cuando se da una actuación deportiva tendremos que preguntarnos entonces si un evento de estas características

con esas funciones y si es conveniente que eso sea así y dónde está

y qué modelo económico vamos a plantear y qué tipo de economía trae un deporte de estas características

preguntas tenemos que hacernos respuestas de cara a ver el sentido de la iniciativa

pero es que también hay otros eventos en bilbao que nos permiten hacer esto por ejemplo la aste nagusia que tiene

componente otra forma de hacer las cosas y que responde a otro modelo económico y esto tiene que ver con lo que decía antes con el modelo de ciudad el modelo el modelo de país que queremos hacer yo sé que y lo he dicho antes

esta apuesta nos lleva a que los usos de san mamés estén más cerca de otras ciudades que de las nuestras pues porque nos miramos más a lo de fuera es decir trayendo cosas de fuera dejando un poco de lado lo que tenemos y yo me hago una pregunta por qué no hacemos en ese uso cultural que se puede hacer por ejemplo

por ejemplo también se podría hacer un trabajo de esas características y llegando

yo quiero señalar también que en el aspecto económico hay que tener en cuenta cómo se hacen los contratos qué tipos de condiciones se ponen a los trabajadores cómo

esos contratos la iniciativa tampoco señala absolutamente nada en relación con esta cuestión y hablando de esto y de san mamés barria pues tendríamos que preguntarnos por los empleados de san mamés por ese modelo que queremos hacer habría que ver cómo encajamos a estos txapelgorris

nahi dodazenak cuando no erosionen la filosofía del club ni de nuestro pueblo cuando no contribuyen a perpetrar

en los que no estemos de acuerdo y cuando no sirvan para poner en valor euskal herria su cultura lo que somos y lo que queremos ser y cómo queremos que nos conozcan esta es nuestra posición lehen

gracias de nuevo señora presidenta bien con relación al partido nacionalista vasco

llegado a un acuerdo efectivamente no son incompatibles nosotros lo que pasa es que pedíamos una solicitud muy concreta y determinada que es compatible con lo que ustedes pedían que se pueden traer otros eventos bueno luego contestaré

y claramente a la señora romero darle las gracias porque es verdad que ella mostró su acuerdo desde el minuto uno darle las gracias porque es la única que viene vestida de rojiblanca hoy aquí entonces y sobre todo porque las cuestiones que ha señalado

yo estoy de acuerdo con ella y también con lo que he dicho de que hay que estar vigilantes para que esto realmente se cumpla y que de la misma manera que yo presentaba la iniciativa como que no era partidista pues en ese mismo sentido quiero decir que esperemos que luego a la hora de decidir si se trae o no se trae o cómo se trae o cómo se gestiona también

al margen con relación a bildu pues efectivamente hay que hacer planificaciones yo puedo estar de acuerdo eso puede ser objeto de otro debate de la misma manera que puede ser objeto de otro debate el modelo económico y social

seguro que si nos ponemos a hablar sobre la aste nagusia pues también por ejemplo las corridas de toros son de las cosas que más atrae a la aste nagusia y seguro que todos no están

que eso es absolutamente planteable es verdad que es el athletic el que lo tiene que solicitar es verdad que el athletic tiene algo que decir porque es el que tiene la gestión del campo pero es verdad que para que el athletic lo haga

pueden plantar el tema para que luego el athletic a su vez también en su caso y entre sus socios así lo plantee

del mundo ya vamos encarrilando la situación y creo que vamos a llegar a más finales lamentablemente perdimos dos finales a ver si jugándola en casa conseguimos ganarla

ya merecería la pena y con relación a la señora garcía señora garcía usted es que hasta en la critica que me ha hecho inicial ha dicho exactamente lo mismo que ayer dijo la no aquí lo de pasarse discursos es bastante común porque la señora la representante del partido nacionalista vasco

el señor consejero esto del reciclaje de los discursos

usted dice que si no tengo más preocupaciones oiga mire eso es coger el rábano por las hojas y hacer una demagogia fácil y barata de manera absoluta

de todo tipo de todo tipo este es un evento deportivo pero como le decía no solamente tiene el interés deportivo como tal sino en interés económico el interés económico para la ciudadanía y usted dice

yo le digo las de rugby que también es un deporte que en euskadi

a partidos a finales a bilbao cuando hay fútbol cómo está bilbao usted fue en la final de rugby usted le preguntó a los hosteleros qué opinaban que estaban encantados usted preguntó a los comerciantes

porque yo sí y estaban encantados

estaban encantados encantados a parte de la ciudadanía en general que la verdad el bullicio que había en bilbao durante mucho tiempo siempre que esté controlado la seguridad

pongo aquí a una final europea de clubes lo del masculino se lo ha puesto usted que tiene

pero le diré que nosotros nuestro grupo político fuimos

enmiendas en este presupuesto para ayudar a clubes femeninos de elite clubes femeninos de elite para poder participar competiciones europeas es que lo que no se puede decir es que porque presentamos una iniciativa concreta no nos interesa lo demás o que porque presentamos una iniciativa y yo he hablado del deporte masculino no nos interese

si usted le vale bien pero creo que no aguanta la más mínima prueba del algodón y usted hablaba de otros eventos pues claro si se pueden hacer

pueden plantear hacer otros eventos pero es que están se lo he dicho están autorizados este es el convenio que se firmó y en el punto cinco pone otros usos del campo

a cada uno de los socios siguientes entre los que está la diputación foral el gobierno vasco el ayuntamiento para usos determinados recogidos en los términos y condiciones de acuerdo con el anexo cuatro eso es porque nosotros hemos hecho un planteamiento de un evento porque creemos que es un evento bueno para bilbao bueno

para bizkaia bueno para euskadi y usted hablaba del bilbocentrismo mire yo nací en basauri también es verdad que los de bilbao nacemos donde queremos pero vamos me siento

lo cual no quiere decir que si se plantea en otro no lo vaya apoyar

la misma manera contundente amaitzen joan mesedez sí voy acabando como la señora romero que a pesar de hablar de bilbao pues no ha tenido ninguna duda

es que una cosa no quita la otra y creo que intentar quedarse en la superficie para no hablar de si te parece bien o no te parece bien

y bien determinada que no implica ni no apoyar al deporte femenino ni no apoyar a otros eventos que se puedan hacer en bilbao muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

porque creo que es un tema en el que en base podemos estar de acuerdo yo en ningún momento he dicho que no estuviéramos de acuerdo

sobre lo que es prioritario para ustedes y sí usted me ha preguntado

dio la casualidad de que yo estaba en un concierto a nadie le importa en qué concierto y la verdad no voy a contar tanto pero

y tuve además y luego después del concierto estuve en diferentes bares

pero yo lo único que le he dicho es qué tipo de contratos si

no he hablado de nada más tampoco iba a salir pero claro

a darles a ustedes la razón y yo no puedo coger mi cuota

y no lo voy a hacer pero ustedes lo ponen muy difícil a veces

con todas las conversaciones acaban en bilbao todos los eventos tienen que ser en bilbao con respecto a la demagogia creo que eso es demagógico

en precampaña es demagógico pero es evidente y además creo que es bueno eso que tenemos diferentes conceptos de la demagogia y creo que no solo en esto al margen de eso estoy de acuerdo señora goirizelaia con el tema

lo que yo he venido a decir que este tipo de eventos la promoción y la imagen que da de una ciudad habrá que replantearse si es lo que nosotras queremos ofrecer y si realmente eso

a una parte también es verdad que el proceso participativo tiene que pasar por la asamblea de socios

si ustedes hablan de que es el mejor equipo del mundo entiendo que no habrá ningún problema en que haya un proceso participativo ningún problema

en desacuerdo con este tipo de eventos sino con el planteamiento de cómo se realizan de lo que suponen y de los impactos que también hay impactos negativos y de cómo planificamos esos impactos tenemos el ejemplo de la final four y el tema y la cuestión de los contratos y la cuestión de las voluntarias

para trabajar gratis sin ningún tipo de contrato

jugar a yo soy más basconista que ustedes del athletic aun así eso no quita criticar que un evento vulnera ciertos derechos con la afición con el sentimiento y con esas cosas identitarias que a ustedes les gusta poner sobre la mesa
para no hablar de las cosas que de verdad yo creo que importan así que muchas gracias eskerrik asko garcía

yo tampoco iba a salir peo obviamente algunas intervenciones
sí las voy a contestar y además de una manera mucha más seria aunque haya también

caben estas celebraciones estos eventos que los deportivos redundan en beneficio de la ciudadanía

de un modelo de turismo determinado dentro de un modelo económico determinado eso es lo que trabajamos

que en ese sentido se puede seguir trabajando que si se da por fin la consecución se haga de la mejor manera posible lo he dicho antes también en relación

a la seguridad o en cómo revertir esos beneficios eso desde luego

tampoco lo conozco yo lo que digo es que se impulse ese objetivo con respecto al

es acusar a un partido que ha dicho que sí y que ha votado que sí a la celebración para pedir o instar que se celebre es evidentemente acusarnos de demagogia a nosotros por votar que sí

y además que no va a entrar en frivolidades de cómo ponernos la ropa mire yo para empezar no soy del athletic

que llevo en el pleno porque entonces si no iría de negro casi todos los jueves

eso para empezar no se me ocurre para mí esto era un tema serio

los socialistas en el ayuntamiento de bilbao y en las juntas generales de bizkaia y que es compatible con otras cuestiones que se han planteado

por parte de la portavoz de eh bildu del partido nacionalista vasco y también de podemos en su enmienda que ahora ya no se refiere para nada al proceso participativo yo insisto

trabajarse en el consejo citado por lo tanto

yo lo que he dicho es que es bueno que lo pensamos y que lo hacemos igual en todas las instituciones con presencia en el consejo

no cabe ningún tipo de bromas el athletic es uno de los clubes mejores que hay en euskadi pero obviamente también está el alavés

la real que va el séptimo el eibar que va el décimo y el último que va el athletic pero también el décimoprimero ese es el resultado pero tenemos muchos equipos

ojalá se celebre ese campeonato de verdad de clubes europeos yo

lehenengo eta behin señora garcía proceso participativo pues efectivamente la asamblea de compromisarios del athletic es donde se hace el proceso participativo y como el athletic es el que tiene que pedir

en ese proceso participativo podrán tener opinión

pero se tendrá que tener en cuenta esa opinión seguramente en esa asamblea

pero vamos a hacer las cosas donde se tienen que hacer y como se tienen que hacer urrutia jauna

vamos a ver mire aquí coincidimos en bastantes cosas usted me ha dado la razón en muchas cosas yo le voy a dar la razón en alguna otra en que vamos a ganar la siguiente final en que vamos a ser los mejores en eso le voy dar la razón

con un toque un poco electoralista y sustituyendo en el quehacer a su candidata a la alcaldía de bilbo que bueno que en esto temas y en otros muchos está bastante lejos de la realidad

que tiene a su alrededor entonces usted está intentando hacer ese trabajo de bilbaína de pro de vizcaína de pro porque las candidatas que tiene

complicado para hacerlo y efectivamente hay que reconocerlo que eso lo ha hecho usted

al ayuntamiento y a la diputación pues bueno

la clasificación es circunstancial el athletic quedará por encima de todos

y una de las empresas más importantes de euskadi como es euskaltel

pero no como más de uno y de una podría pensar del equipo ciclista al que luego me referiré

y que la voy a traer aquí a colación porque creo que tiene relación con el tema y tiene moraleja

y se dio un capricho se gastó un pastón se gastó tal pastón

así que le dijo bueno como se veía a la legua que era cara le dijo mil euritos

esta va a vender la bici por cuatro duros entonces dijo

llámale a unai que era su compañero de ciclismo y pregúntale a qué precio la tienes que vender

antes de venderlas porque si no se sabe el valor de las cosas se pueden malvender

cuál era el valor de euskaltel de las acciones que estaba vendiendo y de la red de fibra óptica

en venderlas en malvenderlas le podía haber dicho sí también

patxi patxi qué estás haciendo patxi en dos mil doce

el señor lehendakari patxi lópez vendió malvendió las acciones que estaban en posesión del gobierno vasco de euskaltel y malvendió la red de fibra óptica

desencadenó un proceso cuyas últimas consecuencias estamos viviendo

los últimos días de euskaltel entendida como empresa vasca pasaden otsailaren zazpian

el partido socialista y el partido nacionalista vasco aprobaron en el año dos mil quince ante una moción

considera oportuna la salida a bolsa de la empresa euskaltel sa eta klaro hori egokia baldin bada burtsara ateratzen bazara

no es suficiente con estar preocupado no es suficiente con confiar en que las cosas vaya bien no es suficiente con decir que espero que se mantenga el arraigo

decir que es prematuro tomar una decisión sobre la compra de acciones por parte del gobierno vasco

después de que fracasara el primer intento de ope cuando orange había anunciado que también quería hacer una ope cuando zegona estaba reuniendo el dinero para comprar euskaltel

tome una decisión sobre la toma o no de participaciones de euskaltel

de cien años que después de ochenta de novios uno le pide matrimonio al otro y le dice no crees que nos estamos precipitando pues no no es prematuro

su línea de intervención en una empresa estratégica importante para un sector como el de las telecomunicaciones y fue creada con impulso público no solo no es prematuro sino que llegan ustedes demasiado tarde

un mes más tarde porque si el gobierno vasco hubiera reaccionado a las primeras intentos de operaciones si el gobierno vasco se hubiera posicionado como un agente firmemente enfrentado a esos intentos de opa o de adquisiciones parciales sabiendo cómo funcionan los mercados probablemente hubiera dificultado la operación simplemente con manifestar su intención de oponerse

porque hubiera encarecido el precio de las acciones porque hubiera disuadido a aquellas personas que han prestado el capital a zegona de participar en una operación que sería más complicada en términos financieros pero ustedes han quedado sumidos en la pasividad

hacer la estatua mirar lo que pasa decir que están preocupados y no tomar decisiones y ustedes son el ejecutivo y al ejecutivo le correspondería intervenir creo que cualquiera que sepa un poco de política o que me conozca un poco sabrá que el señor ardanza no es santo de mi devoción en términos políticos

que bajo su gobierno se dio el impulso político para crear euskaltel hubo visión de futuro

que ocupó el liderazgo del sector de las telecomunicaciones pero ese impulso esa forma de ver las cosas esa forma de ver el papel del gobierno para mí ya está agotada en el partido nacionalista vasco no es desde luego

alguien le plantea crear una empresa pública y buscar para ello la implicación de kutxabank de las fundaciones

y llevar un liderazgo en un sector determinado porque se prevé estratégico

gertatzen da gertatzen dena eta euskaltelen gertatu daitekeena mención aparte desde luego merece el papel de kutxabank porque kutxabank ha fallado a este país nos ha vuelto a fallar

ha desinvertido en empresas importantes de este país mientras se embarca en aventuras incomprensibles como cajasur

dice cuando le preguntan por la cuestión de euskaltel que bueno que bbk no es accionista mayoritario en todo caso kutxabank y que tampoco es mayoritario

cuando en dos mil doce se privatiza parcialmente euskaltel

kutxanbank garantiza con el cuarenta y nueve coma nueve por ciento el arraigo pues vaya garantía de kutxabank si luego se vende esa participación no se garantiza nada kutxabank nos ha vuelto a fallar kutxabank tiene hay una responsabilidad

y si el señor erauzkin el presidente de euskaltel se encoge de hombros y si gregorio villalabeitia el presidente de kutxabank se encoge de hombros y si la señora tapia y el señor erkoreka se encogen de hombros

confía se preocupa pero nadie es responsable de nada

estamos sumidos en un estado de irresponsabilidad y mientras tanto euskaltel

y todo el mundo encogiéndose de hombro diciendo esto a mí no me mires y estamos hablando de que hay responsabilidades sí pero no es la cuestión principal hoy determinar esas responsabilidades

pero más que buscar los responsables vamos a tratar de buscar las soluciones y la propuesta que euskal herria pone encima de la mesa a través

y de kutxabank es una propuesta para buscar soluciones a la pérdida

si alguien no hace algo y yo no sé lo que van hacer agentes terceros pero la función de este parlamento es controlar al gobierno y hacer peticiones al gobierno

para que el gobierno compre acciones de euskaltel y lo haga en compañía de kutxabank euskaltel vale esta mañana en bolsa

zegona tiene el quince por ciento y quiere hacerse con ciento doce millónes

kutxabank tiene el veinte kutxabank puede tiene recorrido sin declarar una opa por la totalidad de las acciones de llegar hasta el treinta por ciento lo que supondría una inversión de ciento cuarenta millónes un diez por ciento aproximadamente del capital el gobierno vasco podría adquirir un cinco por ciento en total un quince por ciento doscientos diez millónes

pero como decía anteriormente la mera declaración de intenciones de entrar en esta batalla probablemente

se repensara su actitud porque no iba a ser una batalla fácil estamos hablando también de la posibilidad de buscar socios pero socios responsables no especuladores

socios industriales socios tecnológicos socios del sector de telecomunicaciones que se hagan con una parte del capital de euskaltel no para especular

empresas que a todo el mundo nos viene a la cabeza como una teleco vasca

ha compartido andadura en los últimos años eso sí son el tipo de socios que se puede buscar

que se puede tener no desde luego fondos especulativos y siempre manteniendo una participación mayoritaria pública o semipública que permita mantener el control social y el arraigo

parlamentario aun estando de acuerdo con la iniciativa original creíamos

que necesitaba una serie de elementos o de cuestiones que en nuestra opinión

se deberían abordar cuando menos en el debate aunque la iniciativa traiga una proposición

bastante concreta y en ese sentido caminaba nuestra enmienda a la totalidad introduciendo la cuestión de la banca pública que finalmente se incluye en la transacción a la que hemos llegado

en nuestra opinión el objetivo o cuál debe ser el objetivo en nuestra opinión a la hora de la intervención pública en las empresas que consideramos o que consideremos

no debe ser otro que la presencia pública en la propiedad y en la gestión de las mismas para garantizar que estas puedan realmente servir al país al interés general y no a los intereses privados de propietarios o accionistas de turno porque aunque compartimos la posición

en nuestra opinión esto no es suficiente para garantizar ningún compromiso con el país por parte de esas empresas nosotros compartimos que la defensa

pero pensamos que esto aunque condición necesaria no es ni mucho menos condición suficiente para garantizar que dichas empresas estén al servicio del interés general

euskaltel hoy aún tiene sede y centro de decisión en euskadi está en riesgo como bien apunta la justificación que ha hecho el señor

en euskadi y sin embargo hoy euskaltel es una empresa privada cuyos objetivos son la obtención de beneficios privados y punto su compromiso con el país

está subordinado a los intereses particulares de una mayoría de accionistas que son entidades financieras capitalistas de carácter además en buena medida especulativo por eso décimos que no es suficiente con el arraigo no es suficiente con que el centro de decisión o la sede estén en euskadi tal vez sea necesario sí pero no es suficiente si el objetivo es como se plantea en la iniciativa original

compartimos que la empresa tenga un compromiso con el país por eso para nosotros es importante hablar de participación pública

control público en empresas estratégicas y por eso planteábamos la necesidad de herramientas financieras públicas que sean capaces de garantizar inversiones en empresas estratégicas para garantizar no solo el arraigo sino el servicio real el servicio social a la sociedad vasca

nos parece fundamental cuando hablamos de una empresa como euskaltel que además

estratégica es una empresa creada con impulso público y creada en buena medida con capital público con dinero de origen público

público dinero como le gusta decir a la derecha que viene de nuestros impuestos que por cierto fundamentalmente aportamos las y los trabajadores por eso en opinión de nuestra coalición euskaltel nunca debería haber dejado de tener un control público y una participación contundente

por su carácter estratégico en las telecomunicaciones y por su origen con gasto de dinero público pero lo cierto es que la realidad actual de euskaltel

de esta que nos gustaría a nuestro grupo parlamentario

es en nuestra opinión el resultado de una política concreta una política claramente neoliberal esa que ustedes muchas veces algunos grupos

de la izquierda pues bien pensamos que no es un mantra

de una política donde la administración pública actúa en última instancia al servicio de intereses privados bajo la falsa argumentación de las bondades del llamado

políticas como esta son las que nos han llevado a la situación actual en el caso de euskaltel si el objetivo de la empresa euskaltel era en origen

de la proposición que nos ha presentado el señor casanova lo cierto y estoy seguro que convendrá conmigo es que

tenemos que decir que el objetivo actual de esta empresa es simplemente obtener beneficios para sus propietarios ese y ningún otro eso es lo que explica que euskaltel haya realizado duros procesos de ajuste en el empleo y en las condiciones laborales de su plantilla

la plantilla de euskaltel se ha reducido en diferentes actuaciones de recorte que han adoptado en ocasiones la forma de externalizaciones o subcontrataciones

de euskaltel la dirección de euskaltel ha actuado guiada con objetivos exclusivos de rentabilidad para los accionistas y el cobro de bonus para directivos

y todo esto se ha hecho estando el centro de decisión en euskadi pero en manos privadas y en favor de intereses privados que es lo realmente importante para nuestra coalición en manos de quien estén este tipo de empresas y sobre todo es importante en caso de empresas como euskaltel

de lo público en su origen en su gestación porque pensamos que lo que nació con dinero público no puede acabar siendo un negocio privado para algunos por eso a nuestro grupo nos parece que las políticas públicas a este respecto han de garantizar control público sobre este tipo de empresas y que para ello la banca pública

es fundamental en nuestra opinión que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros reducir el imponente poder de la oligarquía financiera

a sectores productivos relevantes para intervenir en los sectores estratégicos en favor del interés general pero para todo esto hacen falta gobiernos que compartan esta filosofía y esta política

parlamentarios la comparten el gobierno vasco no la comparte creemos que la prueba es precisamente euskaltel creemos que es un ejemplo claro de una empresa creada con impulso y dinero público en un sector estratégico que ha acabado siendo o convirtiéndose en una herramienta al servicio de intereses económicos privados

con puertas giratorias con bonus a directivos con explotación laboral con todas las características típicas de este tipo de procesos

estén en euskadi pero si esto es para que estén realmente al servicio del país y no al servicio de intereses particulares porque si no haremos

no sé lo que hace usted nosotros no hacemos esas cosas nos dice que hay algunos grupos que no comparten lo que usted plantea nosotros

los paraísos comunistas y cómo se vive ya lo conocemos usted ha aprovechado que el pisuerga pasa por valladolid dice queremos un banco público vasco vale ya está

y me quedo ahí y yendo a la iniciativa yo me voy a hacer señor casanova puedo compartir gran parte del relato histórico que ha hecho

pero también hay que tener en cuenta que el dos mil doce era el dos mil doce y hoy estamos en el dos mil diecinueve ni las circunstancias son las mismas ni el valor de las cosas

porque el fondo de la cuestión nosotros ya planteamos en su día

incluso le apoyamos al gobierno hace dos años cuando planteó crear un fondo para invertir en empresas que todavía estamos por ver qué ha pasado con ese fondo señora consejera

dos años y medio y esto fue anuncio de inicio de legislatura

hasta hoy hasta hoy que se suponía que ese era el fondo

podría tomar posición en empresas estratégicas

continúen aquí por lo tanto nosotros ya estábamos en eso pero es que nosotros en su día cuando se hizo la fusión cuando se hizo la fusión nosotros ya plateamos que las participaciones del banco

fundaciones pero por lo que sea no se hizo pero además entendíamos que era bueno porque además era bueno que las fundaciones tuvieran varios ingresos distintos y no dependieran todos sus ingresos

sino que era mejor para las propias fundaciones tener repartidos sus ingresos pero bueno no se hizo

las obligaciones de kutxabank porque incluso en la propuesta inicial el señor casanova reconoce porque nos dice

lo que no sé si legalmente hay obligación o no pero es evidente que le penaliza económicamente a kutxabank tenerlo con lo cual o se deshace o sale penalizado el propio banco pero por qué estamos hoy aquí a lo que venía porque aquí hay cierta contradicción es decir estamos aquí

que dice quiero ampliar mi participación en un doce por ciento y entonces de repente

y de repente suben las acciones de una empresa que cotiza en bolsa

que supongo que el rumor lo sacaría otro de los socios que dice así subo el precio de la acción y zegona me tiene que pagar más pero claro cuando nosotros venimos aquí

qué estamos haciendo porque estamos especulando es una empresa que cotiza en bolsa señor casanova como usted ha dicho la bolsa funciona como funciona y las reglas son las que son entonces ahora vamos a tener por un lado hasta ahora es que tal y ahora resulta que el gobierno vasco y tal con lo que se aprueba aquí va a ser otro competidor que va a elevar el precio de las acciones que luego vas a tener que comprar o recomprar tú mismo con lo cual

empiezo a no verlo digo para los vascos claro qué estamos haciendo especular

elevar o bajar el precio de una acción que cotiza en bolsa claro

estamos en las mismas y yo me voy a quedar con sus datos se los compro más o menos mil cuatrocientos millónes de euros la mitad son setecientos porque adquirir

para decidir dónde que queda es el cincuenta por ciento o sea setecientos millónes de euros oiga iberdrola es estratégica es importante para este país

tiene más empleos que euskaltel unos miles más aporta más dinero a proveedores vascos unos cientos de millónes de euros más

tenemos que comprar el cincuenta por ciento para que se quede y garantizar que esté porque esto es lo que se está planteando aquí

ni de dónde va a salir aquí el dinero bueno el señor hernández lo tendría claro

y luego pasa lo que pasa lo que ha pasado en todos los paraísos comunistas que hemos conocido que se va todo a pique nosotros en esta proposición

apuesta y cuál es nuestro planteamiento ya planteamos en su día en este parlamento y ya aprobamos que las fundaciones entraran a formar parte de ese fondo ya apoyamos que se hiciera ese fondo

y no sé si es que para el gobierno vasco ha dejado de ser una preocupación a nosotros nos pareció muy bien

uno considere estratégica una empresa o cuál no considera estratégica yo creo que en este caso de las que estamos hablando es evidente que son empresas estratégicas

porque en este caso estamos hablando de empresas tecnológicas que lo importante es la tecnología que se pueda desarrollar aquí si es que al final terminamos desarrollando alguna en esta materia

presidenta consejera consejero buenos días efectivamente señor casanova usted decía

participaciones de euskaltel pero hay algo que

no me deja de sorprender porque la decisión de vender no la adoptó el señor

la adoptó la comisión de hacienda que dio el visto bueno a esa venta de participaciones aquel

del año dos mil doce tiende usted o bien a no votar

de la democracia últimamente y me parece que ningunear en este caso al parlamento vasco

por lo tanto la comisión de hacienda fue la que dio el visto bueno para que se pudieran vender esas acciones y mire los socialistas vascos enfocamos el asunto que usted nos ha traído desde dos ámbitos o dos planos complementarios desde el interés

que operen en euskadi y también en el mercado global también desde el ámbito de la necesidad o de la oportunidad que supone para el gobierno vasco participar con acciones bien de forma directa o de forma indirecta en ese juego de necesidades de que las empresas estratégicas se queden en euskadi y también

que también debatimos aquí además hace un año exactamente fue el veintidós de febrero y estamos a veintiuno pero del año dos mil dieciocho efectivamente usted lo ha dicho

una empresa a tener en cuenta porque ha sido una empresa y es una empresa tractora en euskadi por sus inversiones por sus compras en empresas vascas por sus aportaciones a la hacienda en euskadi aunque es verdad que también algún que otro tirón de orejas como en el caso de los bonus o alguna recomendación y opiniones por parte del gobierno vasco también se han tenido que dar desde las instituciones para reorientar algunas de sus acciones que no nos parecían

los socialistas vascos siempre hemos defendido y hemos apostado por la implicación del gobierno vasco en el mantenimiento del arraigo de las empresas que sean estratégicas en euskadi que sean empresas tractoras pero siempre dentro de unos límites

además de la ley también el sentido común y también la capacidad económica de un gobierno y por eso se han hecho pronunciamientos expresos en varios momentos a lo largo de la legislatura pasada

en el devenir en momentos que tienen que ver con el devenir de esta empresa hace un año ya debatíamos como le decía varias iniciativas con relación a la participación del gobierno vasco en esas empresas que tienen carácter estratégico debatimos el uno de febrero una pnl

concedida a empresas vascas un día más tarde hubo una interpelación de euskal herria bildu

en el fomento de la inversión pública en empresas del sector industrial de euskadi posteriormente se sustancia esa interpelación en una moción que fue debatida el veintidós de febrero

tuvo lugar una comparecencia de la consejera de desarrollo económico solicitada por parte del grupo populares vascos y también por elkarrekin podemos sobre la participación del gobierno vasco con la compra que había hecho del uno coma veinticuatro por ciento en la empresa por tanto son iniciativas que directamente estaban relacionadas con el tema que hoy trae aquí porque usted ha explicado el caso

entonces hace un año hablaba de euskaltel y hablaba de otras diecisiete empresas estratégicas vascas en las que el gobierno vasco debiera de participar para que mantuviese el arraigo y además se fomentase

y mire de aquel veintidós de febrero sacamos una conclusión aprobada por la mayoría de esta cámara

entre el grupo nacionalistas vascos el grupo socialistas vascos y ustedes una enmienda que decía

y decía el parlamento vasco muestra su preocupación ante el proceso de venta de participaciones empresariales que está realizando la entidad bancaria kutxabank instando a este banco y a las fundaciones de las cajas a que no lleven este proceso de desinversión más allá de los límites preceptivos que marca la normativa europea y a que busquen los modos más eficaces en colaboración con las instituciones vascas

sigan en manos vascas decíamos también y aprobamos el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que el fondo de inversión público privada priorice el interés público general sin dejar a un lado las imprescindibles demandas de rentabilidad y siendo los criterios principales

de la gestión y para ello este parlamento insta al gobierno vasco a que cuando incorpore socios privados a este fondo garantice que compartan estos objetivos por último instábamos en esa enmienda que se aprobó a la reflexión en relación con el sistema de fondos con dinero público para poder evaluar el impacto generado y posibles reestructuraciones de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de industrialización dos mil diecisiete dos mil veinte y hacer uso por el gobierno vasco de los derechos

para hacer así un seguimiento de la actividad y garantizar que tanto desde la perspectiva de los intereses generales

se desarrolla la cuestión de una forma adecuada es decir mirábamos y hablábamos de la reorientación de la reestructuración de esos

financieros yo creo que se ha hablado y además se ha expuesto públicamente la necesidad no tanto igual de ser un socio financiero más en esta empresa que esta exclusivamente en manos de socios financieros sino que se trataba de intentar buscar

debieran por parte del gobierno vasco adquirirse una serie de acciones lo lógico no descartaba el gobierno en palabras de la propia consejera

se incluyese y no dejarlo todo al albur de esos socios financieros y a mí me parece que esa es la actuación

la actuación necesaria porque en su enmienda hablan ustedes siempre de unos máximos que todo aquello que venda kutxabank lo compre el gobierno oiga ya y de dónde

y cuando ya hablamos hace un año de esos instrumentos financieros que tenemos que ese era en aquel entonces el socade hablábamos también de fondos de capital riesgo

es decir tenemos los materiales tenemos la estructura se nos ha dicho por activa y por pasiva

de finanzas es el eje que va a vertebrar toda la actividad financiera y las participaciones accionariales del gobierno se nos decía cuando estábamos hablando

también en concreto con los fondos estratégicos y por lo tanto estamos en esa misma circunstancia por lo tanto yo creo que su enmienda

es una vuelta de tuerca más en este caso es euskaltel mañana puede ser igual otra pero en este caso euskaltel y una vuelta de tuerca más aquel acuerdo

tan vigente como aquel veintidós de febrero del año dos mil dieciocho tan vigente o más porque creo que allí imperó el sentido común y porque creo que allí imperó también término llamado colaboración del que hablábamos en la enmienda que aprobamos porque no podemos instar a kutxabank a que no desinvierta cuando la normativa europea le obliga a ello porque estamos hablando usted lo ha dicho dos mil seiscientos millónes de euros que en fin teniendo en cuenta los presupuestos de este año no se han aprobado por parte de los grupos

pues me va a contar usted de qué estamos hablando en cuanto a cantidad económica para poder presentarnos con seriedad y con rigurosidad a

cómo eso es imposible y usted yo creo que es el primer consciente

no ha descartado no ha descartado y para que quede bien claro que pueda ser oportuno el intervenir a través de la compra de participaciones lo que no entendemos que es del todo preciso y ajustado

ir a coger todas las acciones que pueda dejar kutxabank ir al todo por el todo y de esa manera solucionar el tema del arraigo porque incluso puede haber un pacto entre socios

de euskaltel y por lo tanto el arraigo estaba digamos en este pacto entre socios estaba asegurado por lo tanto no

y otras formas de actuar para que no se produzca el desarraigo de las empresas tractoras y estratégicas que compartíamos con usted

compartimos aunque no vayamos a apoyar su iniciativa compartimos que es necesario que sigan manteniéndose en euskadi por el bien de la economía vasca no tanto no de la empresa sino de la economía vasca y por la repercusión que tiene

hablando por eso mi grupo le va a solicitar si tiene a bien la votación por puntos de su iniciativa

es directamente algunos de los que también aprobamos aquel veintidós

votar a favor nada más y gracias eskerrik asko corcuera anderea

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor casanova yo tengo un amigo que le pasa lo mismo que al suyo

no hay tabla esquí patín que no tenga

si me pasa algo nunca lo vendas por menos precio del que yo te he dicho que me ha costado

en su práctica deportiva y que esa llamada de la que hablaba usted nunca se dé en cualquier caso si tuviese que darse esperemos que sea

batez ere esaten denean el parlamento insta al gobierno a kutxabank y a las tres fundaciones bancarias propietarias de este banco a adoptar medidas para garantizar

y para garantizar el compromiso de esta empresa con el país ni horrekin bat nator honaino guztiz ados baina gero esaten duzue y a que para ello

adquieran un numero suficientes de acciones de euskaltel si hubiese sido a que pongan en marcha otras actuaciones entre ellas la compra de acciones pues no hubiesemos tenido ningún problema baina zuk aldez aurretik ia etxeko lanak jartzen dizkiguzue o sea

hasieratik las necesarias para garantizar el compromiso con el país

cuántas acciones son necesarias para que una empresa siga comprometida con el país

y a partir de ahí que hay que llegar a garantizar el cincuenta y uno por ciento del accionariado para que esta empresa se quede aquí qué tiene de especial esta empresa respecto a otras

y si el gobierno tiene que invertir todo ese dinero en comprar acciones de esa empresa

a por mí en este caso a quién le quitamos le quitamos a las ikastolas le quitamos a la acción social le quitamos a la vivienda de dónde sacamos ese dinero

porque a mí usted ha hecho la cuenta pero no me ha quedado nada claro cuál es ese precio final decía usted que hay que saber en qué precio se vende yo le digo que también hay que saber

y estamos por ver si a cada empresa que le sale alguien

acto seguido el gobierno tiene que salir a comprar esa parte para garantizar usted se imagina la cola que va a tener esta señora en el despacho usted se imagina la de novias que les van a aparecer a todas las empresas

que son estratégicas en este país hombre es que si no tienen se las van a inventar ellos se van a inventar los fondos oiga que me viene un fondo que me viene a comer que me tengo que marchar señora consejera por favor

que hay que pagar que hay que comprar y tendremos que valorar en su momento

esta empresa es buena esta sí esto es bien esta empresa es no

porque como le digo la cola puede ser increíble mire el gobierno tiene voluntad de que euskaltel mantenga el arraigo

y no se renuncia a hacerlo la consejera ya ha dicho que no renuncia a poder comprar esas acciones pero no se limita únicamente a eso es mucho más importante garantizar el arraigo

o tiene que ser necesariamente por encima del cincuenta y uno eso en la actualidad ya se produce

a partir de ahora pues habrá que conseguir que se mantenga esa

en el propio pacto de socios que es algo mucho más

si uno no tiene toda la mayoría porque como decía antes no se trata solo de tener sede aquí o de pagar impuestos aquí se trata de invertir aquí y de crecer desde aquí y por eso nuestra estrategia la estrategia del departamento de desarrollo económico en este caso

distintos adaptados a la necesidad de cada empresa pueden ser prestamos puede ser capital riesgo

el parlamento vasco vuelve a instar a kutxabank a que mantenga su participación

en esta transacción a la que han llegado con podemos endurecer en esta parte incluso donde estábamos de acuerdo hasta ahora

para votar a favor en cualquier caso en su redacción inicial estábamos a favor

hasta que se propone que el parlamento vasco inste a que en todos esos casos

el gobierno y las fundaciones bancarias se hagan cargo de aquello que kutxabank debe dejar porque le obliga

la normativa europea en este momento yo me planteo yo creo que a priori

yo desconozco la cuantía de a cuánto van a ascender esas desinversiones y si va haber muchas más de aquí en adelante

pero puedo intuir que no van a ser demasiadas en las actuales circunstancias

que esas desinversiones fuesen cubiertas de alguna manera por las fundaciones bancarias o por el gobierno vasco

pero creo que como premisa general a nadie se le escapa que eso no se puede plantear como una obligación que no vamos a obligar a que todo lo que se quede en el camino sea asumido sin pensar por nadie es decir yo creo que cada fundación bancaria y el propio gobierno vasco deben analizar

y que quizá en algún caso tampoco sea ni conveniente ni posible que esto tenga que producirse siempre y de manera

creo que como en cualquier otro caso como cualquier otro comprador resulta imprescindible analizar la viabilidad de la empresa carácter estratégico la necesidad de participación pública

en cada fundación bancaria en cambio con el tercer punto de su transacción no tenemos ningún problema al contrario creemos que encaja perfectamente con los planteamientos de nuestro partido de este grupo parlamentario y de las políticas del gobierno asimismo

y del que hoy usted parece descolgarse nosotros seguimos defendiendo lo que planteábamos entonces y

grande para nosotros compiten desde euskadi con gigantes en su ámbito euskaltel es una de ellas y algo que para nosotros es grande en el mundo global es de una dimensión pequeña

de adquirir dimensión para poder competir con los demás y no quedarse en el camino

otra cosa es qué tipo de inversiones se necesitan qué alianzas se producen qué adquisiciones se dan o cuáles van a ser las decisiones a futuro necesitamos arraigar empresas sí pero necesitamos que aquellas que están trabajando en un ámbito global y que necesitan ser todavía tractoras en euskadi puedan continuar trabajando

por falta de dimensión ahí sí ahí estará el gobierno vasco ayudando como lo ha hecho siempre

es para nosotros un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas euskaltel es el fruto de una iniciativa pública

porque esa es la labor de una gobierno desde la estabilidad ayudar y llegar a donde el sector privado no puede llegar pero no sustituirlo señor hernández en lo que sí puede hacer amaitu mesedez bukatzera noa legebiltzar buru anderea

señor grajales si para usted lo que está sucediendo en euskaltel es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas me queda bastante

parece que lo entiendo su objetivo es que las empresas vascas de carácter estratégico terminen en manos de fondos especulativos internacionales

también me extraña que el pnv no sepa cuáles son las empresas estratégicas del país

las que cotizan en bolsa no son muchas y yo no creo que tuviéramos muchas dificultades en señalar cuáles son las empresas estratégicas yo creo que estamos dando aquí una muy mala imagen de esta cámara con la forma de la que está transcurriendo este debate estamos ante un problema concreto como decían los clásicos los romanos

el enemigo está ahí fuera y nosotros aquí perdiendo el tiempo como los bizantinos discutiendo el sexo de los ángeles el señor damborenea

ayer unas transferencias eran la descomposición del estado español y hoy la banca pública

luego ya ha mejorado y yo creo que ha dicho una de las frases más interesantes del día para qué estamos hoy aquí

que el hecho de que nos hagamos esa pregunta debería ser obligatorio todas las mañanas a la hora de empezar a debatir aquí un punto para qué estamos hoy aquí

este punto tiene una respuesta muy concreta a esa pregunta estamos aquí para evitar que el centro de decisión de euskaltel se pierda

transaccionada con elkarrekin podemos para que eso sea así se puede disentir en cuanto a la propuesta pero yo tengo aquí muy claro hoy para qué estamos aquí además tengo muy claro que hoy de aquí podría salir una posible solución

y está absolutamente en otra liga y yo además poniendo la tirita antes de la herida y sabiendo que iban a intentar ridiculizar o caricaturizar la propuesta de la inversión en bolsa diciendo cuánto es y ese dinero cuánto es si el cincuenta el cuarenta el treinta no no

he venido con cifras que también supone una proposición que demuestra el realismo de lo que estamos hablando aquí

mover perfectamente son cifras perfectamente asumibles y no hay que quitar de nada si el gobierno ya tiene unos instrumentos de inversión lo han recordado tanto el partido socialista

precisamente sobre esos instrumentos pero no llegamos a un acuerdo para redactarlo en un papel y meterlo en una urna

para utilizar esos criterios para trabajar cuando se diera un caso concreto en que esos criterios y esa hoja de ruta que acordamos fuera aplicable y este es un caso de manual en el

para mantener una empresa estratégica arraigada al país porque en esta cámara aprobamos hace unos meses una propuesta sobre modelo inclusivo de empresa queríamos todos por unanimidad que las empresas vascas se parecieran a ese modelo quién le va a ir a contar al ceo de zegona lo del modelo inclusivo vasco de empresa

es que a mí me entraría la risa o usted señora tapia quién va a ir a donde estos tiburones a decir que aquí en euskal herria

en que no valía para nada más que para salvar el expediente y que luego eso no iba a tener ninguna repercusión concreta y es verdad como decía el representante de elkarrekin podemos que no basta con que las empresas estén radicadas aquí por supuesto que no basta puede haber empresas radicadas aquí que tengan unas prácticas absolutamente indeseables desde un punto de vista social por supuesto que no basta con que estén aquí pero que estén aquí es condición sine qua non para que se puede incidir desde esta cámara y desde esta sociedad en el modelo de empresa que queremos tener

lo que va a pasar no es un simple debate en esta cámara que trascienda luego en un acuerdo o

que creaba empleo aquí que se creó por un impulso público en el que se invirtió dinero

aquello que sea más rentable a corto plazo para recuperar y multiplicar su inversión porque además lo dicen abiertamente así y lo que queremos es que la empresa euskaltel sea otro modelo de empresa vuelven a la caricatura qué tenemos que comprar el cincuenta yo solo les he hecho unos planteamientos hay que ser el accionista mayoritario y luego es verdad que se pueden llegar a pactos con otros accionistas minoritarios para

partimos del veinte por ciento de kutxabank con llegar al treinta y cinco por ciento sería suficiente y esa inversión se puede repartir de forma asumible entre kutxabank y el gobierno vasco a través de sus fondos de inversión o de mecanismo ad hoc que se puedan crear para hacer esta operación

vuelvo a la caricatura a todas a todas las que estén en esta situación

y las desinversiones de kutxabank efectivamente el grueso de las desinversiones

para tapar todos los agujeros y todos los rotos que ha dejado kutxabank en forma de desinversión

pero las que vienen en el futuro que probablemente según todos los responsables de las fundaciones

creo que estamos en disposición de asumir para que ese roto que ya es de considerables dimensiones no se siga agrandando

y termino ya señora presidenta voy a terminar voy a ganarme fama de contar muchas batallitas pero con el cuento de los tres lehendakaris

el señor ardanza creó euskaltel otro

puso euskaltel en las vías de desaparición y un tercero

puede pasar a la historia o a la pequeña historia de euskaltel como a el lehendakari que no hizo nada mientras euskaltel

ustedes hoy con su votación van a elegir cuál de las opciones eligen eskerrik asko casanova jauna

cuestiones ha planteado fundamentalmente mi coalición a raíz de la iniciativa que nos proponía el señor casanova

de manera liviana pero suficiente en la transacción a la que hemos llegado nosotros pensamos en primer lugar que si se van a utilizar recursos públicos en empresas y en empresas que consideramos estratégicas

no ha de hacerse solo para que tengan la sede y el punto de toma de decisiones en euskadi sino para que se haga con

de verdadero servicio social al conjunto de país y una segunda plantear aprovechar la ocasión es verdad aprovechar la ocasión para hablar de banca pública porque pensamos que la banca pública es una buena herramienta financiera para actuar en política

de país más en un parlamento donde se habla tanto de política de país y esto a alguno

el día que yo venga aquí a exponer lo que los comunistas planteamos para la sociedad

alguno sale corriendo claro bueno

que los grupos que sustentan al gobierno están de acuerdo con algunos de los puntos de la iniciativa y si no he escuchado mal han pedido la votación por puntos para apoyar esa iniciativa nosotros sí que pensamos sí que pensamos que kutxabank está llevando una política equivocada y por lo tanto sí que nos parecía interesante lo que se nos planteaba hoy

a los que suele tener tradicionalmente la banca privada porque es verdad que kutxabank está desinvirtiendo

sin ninguna obligación aquí se ha hablado de obligaciones legales no hay obligaciones legales para muchas de las desinversiones que está haciendo kutxabank

puedan perder ese desarraigo del que se habla y sobretodo que esas empresas finalmente solamente tengan objetivos puramente de interés de sus propietarios objetivo capitalistas y nosotros

no lo compartimos todos los grupos de esta cámara pero nosotros sí y por esa razón nosotros nos abstuvimos en aquel acuerdo

porque considerábamos que no garantizaba que kutxabank mantuviese la participación en esas empresas industriales

eso era importante y por eso nos abstuvimos y por eso hoy nosotros volvemos sí con ese discurso que a algunos no les gusta nosotros pensamos que el dinero público que se invierta

tiene que servir para que haya un control desde lo público de esas empresas y empresas que no son estratégicas porque lo decida eh bildu

o de qué es lo que puede pasar si ese tipo de empresas no están no tienen ningún tipo de control y de seguimiento

por supuesto a favor de la transacción a la que hemos llegado en base a esas dos cuestiones que planteábamos dinero público para

que ese tipo de empresas en las que se invierta desde lo público tengan objetivos sociales y en segundo lugar volver a hablar de banca pública que es algo
que a muchos grupos no les gusta oír hablar eskerrik asko hernández jauna

señor hernández no hace falta que me explique el comunismo lo conozco y después de oírle

qué modelo sigue usted para las empresas y los trabajadores el de corea del norte el de china

que es súper bueno para los trabajadores vascos supongo que los grupos que le apoyan al gobierno

que iba a crear este gobierno para invertir en empresas importantes o relevantes para este país pero mi pregunta no era para qué estamos mi pregunta era por qué estamos y estamos porque en la prensa salió una operación en fin

una especulación pura y dura de acciones de euskaltel

que si orange iba a entrar entonces se disparaban luego orange

entonces vuelven a bajar y ahora nosotros hombre le reconozco que esta actuación hoy pues puede volver a revalorizar el valor de las acciones de euskaltel yo no sé si usted tiene yo no tengo no sé si le gusta mucho el color naranja a mí poco

cada uno tiene sus gustos y sus preferencias pero yo no voy a entrar

oiga para mantener el arraigo y por qué no plantean crear condiciones para que

estén contentas de estar y que incluso otras que no están quieran venir aquí y que se arraiguen aquí y que funcionen aquí porque cada vez que hay que plantear a ver cómo queremos o qué condiciones ponemos hay que subir el impuesto de sociedades hay que subir los tienen que pagar más tienen que así no se fomenta el arraigo

y menos con el dinero de otros sí sí y menos con el dinero de otros

claro y pongan ese modelo en funcionamiento en esas empresas si es tan bueno no sé por qué ustedes no crean esas empresas y con ese modelo porque yo les voy a decir lo que está pasando aquí aquí se está jugando al modelo chiringuito

lo que criticaba de kutxabank era la única ampliación para salir del país que fue

para ver si crecíamos un poco usted cree que un banco en europa puede competir

cuánto tiempo cree usted que va durar con los costes compitiendo en europa

de españa y una compañía de teléfonos usted cuánto tiempo le da cuánto tiempo le da ahora no

que ahí coincide con estos señores por qué no creció kutxabank porque había que repartir acciones con otros claro

pero es modelo chiringuito no es un modelo de una empresa viable a futuro económicamente

no no este es el debate de hoy el debate de hoy es queremos empresas modelo chiringuito que se mangoneen desde las administraciones vascas

y desde luego nosotros evidentemente no somos partidarios de ese modelo

y queríamos con más porque había posibilidades de que kutxabank fuera

y ganara más dinero nosotros sí éramos partidarios de eso también con euskaltel pero claro eso significa

pero si esos socios tú les dices no y seguimos con el centro aquí porque mira ganamos más dinero

pero claro quienes no se han preocupado en los últimos cuarenta años salvo de expulsar empresas y empresarios del país que era el otro modelo que había ahora nos van a venir a dar lecciones a los demás

cuántas se han ido que tenían arraigo algunas de más de cien años eskerrik asko

presidenta y brevemente para no aburrir señor casanova usted suele ser muy detallista en la redacción de sus iniciativas y de

bastante puntilloso en cómo quiere que queden redactadas

con elkarrekin podemos en algunos puntos difícilmente podrían entrar los grupos que sustentan al gobierno y lo sabía porque ha dado como le digo esa vuelta de tuerca al acuerdo

el veintidós de febrero del año pasado entre ustedes el grupo nacionalistas vascos y los socialistas vascos y yo me pregunto es que usted lo que pretendía hoy era dejar o intentar dejar en evidencia que los socialistas vascos en este caso no estamos por el arraigo de las empresas estratégicas o tractoras en euskadi no y nada más lejos de lo que es la realidad de lo que realmente el partido socialista de euskadi quiere para euskadi y quiere para las empresas y las industrias vascas porque mire usted

la legislatura pasada se aprobó con el voto en contra en este caso de bildu

estábamos en la oposición relativa a garantizar la vinculación territorial de la empresa euskaltel y decíamos el parlamento vasco insta al gobierno vasco

de modo que empresas como euskaltel manteniendo su vinculación territorial continúen actuando como empresa tractora del resto del sector de forma que además de mantener el empleo actual sigan generando nuevo empleo de calidad en un sector que es estratégico alto y claro

seguimos estando los socialistas en la oposición y entonces aprobamos en este parlamento una enmienda que transamos con el grupo nacionalistas vascos el voto en contra también de bildu y la abstención entonces del partido popular sobre el proceso de venta en bolsa de una parte del capital de euskaltel y decíamos entre otras cosas en lo que se aprobó el parlamento vasco ratifica que resultaron oportunas las autorizaciones concedidas al gobierno vasco el trece de agosto de dos mil doce que usted ha leído antes también

como para la venta de acciones de euskaltel propiedad de la administración general de la comunidad autónoma de euskadi

en tanto supondrá su reforzamiento como operador líder en el sector de las telecomunicaciones facilitará su acceso a más fuentes de financiación y su crecimiento y desarrollo futuros y el parlamento vasco considera que la empresa euskaltel y sus equipos directivos tienen

por el apoyo concedido por esta al nacimiento y desarrollo de este proyecto empresarial y pide que en sus decisiones estratégicas se mantenga la vinculación de la compañía con euskadi y se traduzca en creación de empleo y apuesta por el desarrollo y la innovación

le añade usted la enmienda que aprobamos de seis puntos respecto a la participación del gobierno vasco y de kutxabank o de las fundaciones de las cajas en la toma de participaciones de empresas en este caso de euskaltel o de empresas estratégicas y tractoras para que sigan

algunas de ellas puedan crecer aún más porque también es un problema de tamaño en lo que son las empresas vascas me parece que queda suficientemente claro qué es lo que ocurre aquí qué es lo que está ocurriendo hoy y qué es lo que va a ocurrir de cara con empresas estratégicas y tractoras que se vean en esta situación y es que hay un compromiso del parlamento vasco y también del gobierno vasco en que las empresas vascas tractoras y estratégicas sigan arraigadas en euskadi y eso se puede hacer con participación pero buscando también

mucho con el devenir y el futuro y la permanencia de esas empresas estratégicas en euskadi por eso es importante que tengamos al menos claro y por eso le vuelvo a solicitar la votación por puntos porque creo que daría coherencia a lo que veníamos planteando y una cuestión que ha planteado también el señor damborenea es que no se hablaba del fondo de inversión bueno pues le animo la dación de cuentas que hace el gobierno respecto a las iniciativas el seguimiento de las iniciativas que aquí aprobamos la del primer semestre del año dos mil dieciocho

de administración de euskaltel ni mucho menos no comparto para nada muchas de sus decisiones otras las puedo compartir cuando yo me he referido a lo modélico

actitud modélica de este gobierno y de los anteriores llegando a donde el sector privado no podía y después

que en un momento determinado si una empresa que está compitiendo en el ámbito global y

necesitan no perderse en el camino por la falta de dimensión

como nos planteaba usted en esta propuesta de una manera cerrada con la compra de acciones

gastar un montón de millónes de euros en tener el treinta y cinco por ciento de la compañía y ya veríamos

y no tener ninguna seguridad de que el arraigo

en cambio hay otros medios que permiten como ocurre actualmente que el veinte por ciento

a través de un pacto de socios tenga asegurado

ese arraigo luego esté tranquilo no les vamos a dar ustedes la responsabilidad de decidir qué empresas

si les diesemos a ustedes la responsabilidad de qué empresas son estratégica y cuáles no es decir me refiero

y algunos como decía en mi primera intervención han llegado

dónde estuvieron ustedes mientras el niño era pequeño o adolescente

antes pasó con el lehendakari agirre pasó con el lehendakari ibarretxe ahora pasa con el lehendakari ardanza

como el señor maduro pero sé lo que va a pasar

el casanova del futuro vendrá a esta cámara a decir tapia y urkullu aquellos dos sí que valían

eficiente potente sí que tenían las cosas planificadas y no este mindundi que hay ahora eso va a pasar porque es lo he pasado pasó

los lehendakaris y los consejeros los miembros del gobierno del partido nacionalista vasco son maravillosos

que dejan el cargo mientras desgraciadamente o porque nos toca tenemos que seguir resistiendo resistir en la política de este gobierno

mantener una permanente actitud proempresa

por las empresas que son esos sitios donde aparte de trabajadores también hay empresarios estaríamos buenos si les dejásemos a ustedes

ustedes políticas industriales estratégicas estables y planificadas eso es lo que van a seguir haciendo ustedes con nuestro apoyo para que este pueblo mantenga su músculo industrial bien planificado ahora y en el futuro igual que ayer y si se puede estoy seguro además que está en sus manos será

legebiltzarkideok egun on guztioi decía pablo neruda que el destierro es redondo un circulo un anillo le dan vuelta a tus pies cruzas la tierra no es tu tierra te despierta la luz y no es tu luz la noche llega y faltan tus estrellas

para hablar sí de destierro que no es distinto de la situación de quienes se tiene que ir sin quererlo estamos aquí para hablar del retorno

porque emigrar per se no es una condena la condena es no hacerlo libre y voluntariamente

la condena es también que una vez hecho quieras volver y no te dejen o al menos no encuentres apoyo para poder hacerlo que quieras construir y proyectar futuro de vuelta a casa y encuentres al frente

de ausencia de oportunidades o de exclusión de los apoyos que hacen que de facto no puedas construir tu camino es por ello que hoy queremos poner

sino la emigración y la imposibilidad de retorno como una vulneración del derecho a construir proyectos de vida propios y dignos donde las personas puedan elegir

para buscar oportunidades de un futuro que aquí no han encontrado o que a día de hoy no están encontrando en el año dos mil diecisiete había treinta y uno mil ciento treinta y seis personas procedentes de euskadi registradas como personas con residencia permanente fuera del estado español más de cinco mil ciudadanas y ciudadanos de araba más de diez mil de gipuzkoa más de quince mil de bizkaia

número de personas que para que nos situemos son como la población de irún o como la población de laudio y amurrio juntos como si todo sestao y mundaka

en el año dos mil diecisiete hay un repunte de personas que migró desde euskadi dos mil novecientos treinta y cinco marcharon en el último año hay mil quinientos cuatro niños y niñas cuya familias emigraron desde euskadi

y niños que han emigrado junto a su familia y que no han vuelto bi mila zortzitik aurrera

que el número de personas de nacionalidad española registrada en la seguridad social británica en dos mil quince era cinco veces superior

datos que no se ajustan porque por ejemplo hay quien tiene miedo a darse de alta en el extranjero por el riesgo a perder derechos a la vuelta no obstante no voy a seguir utilizando datos que no sea oficiales así que vuelvo al ine de las dos mil cuatrocientos diez personas que pudieran retornar a euskadi en el año dos mil diecisiete cuarenta y tres por ciento

el treinta y dos por ciento era menor de diecinueve justo edades que prácticamente en su totalidad quedan en el limbo de los programas de apoyo existentes porque programas hay sin duda y no funcionan dos programas desde el ámbito de lo público impulsados por este gobierno que buscan en teoría facilitar que quien quiera pueda volver y que han ayudado en las últimas convocatorias

una en dos mil diecisiete y seis en dos mil dieciocho seis de veintitrés solicitudes a lo loco

pero no parece que haya demasiados movimientos o que al menos desde el año dos mil quince

luego nos echamos las manos a la cabeza porque no hay relevo generacional no digo ya porque las personas no puedan desarrollar sus proyectos de vida y tengan que irse a buscarse la vida al extranjero

lehendakari afirmar que no hay fronteras en el mundo laboral y que en el marco de las empresas en la era del mercado global insta a los jóvenes al exterior y verlo como una oportunidad laboral aunque con el reto de volver considera de verdad

de los datos que he dicho el reto de volver está al alcance de la mano de cualquiera

que salga a explorar mundo para nuestro grupo hay mucha tarea por hacer en todos los niveles institucionales y la tarea que debe ser central porque tiene que ver con la capacidad en este caso

de las que usted hablaba o de poder afrontar el reto de volver del que usted también hablaba

a esta materia en esta cámara sabemos que el gobierno también reconoce

cuál es nuestra propuesta hacerlo comprometiéndonos a reorientar las políticas de retorno hacia la recuperación y garantía de los derechos perdidos al emigrar garantizando el acceso a las políticas de vivienda a las de empleo a las de protección social

eta bermatu behar baitugu porque es su derecho pero sobretodo porque es lo mínimo lo decente tener unas instituciones públicas que estén presentes preparadas

lo hagan más allá de los números es tarea de las buenas administraciones públicas generar posibilidades y oportunidades de retorno para que quien quiera irse lo haga voluntariamente pero de verdad

oportunidades para volver independientemente de su edad de su formación de su profesión o de que las empresas les contraten o no le contraten porque es de construir proyectos de vida

es de poner en el centro las vidas no compartimos desde elkarrekin podemos tener una visión utilitarista de los seres humanos no lo compartimos para quienes vienen y tampoco para quienes se van nosotras creemos que todas las personas tienen valor y tienen derechos y es para ellas para quienes tenemos que hacer política para todas ellas

hay que saber y eso pasa sin duda por evaluar o que hay somos conscientes también de que para ser mejor hay que compartir y que eso implica ceder

hemos apostado desde el minuto uno y trabajado por este acuerdo hemos celebrado y celebramos que todas en todos los grupos hayamos sido generosas y hayamos logrado

no solo de la situación de las personas emigradas sino también de las causas que motivaron esa emigración también instamos al gobierno a que evalúe los programas y recursos para facilitar el retorno

margen de mejora comprometemos que esa evaluación se haga con la con la participación de las instituciones y en la medida de lo posible de las colectividades vascas en el exterior y que se haga antes de acabar el año

que se traigan también antes de finalizar dos mil diecinueve tomando en consideración medidas específicas que eviten que quien no quiera

y comprometemos también una mejora de la recogida de datos que es clave para que se dé una evaluación sistemática de las políticas de retorno incluyendo preguntas que permitan desagregar datos que aporten claves indispensables para la mejora constante

y creo que es un buen acuerdo no es el que me hubiera gustado está claro pero es un buen paso adelante que nos permite parar conocer y avanzar desde elkarrekin podemos estaremos muy pendientes del cumplimiento de este acuerdo y esperamos sincera y honestamente

pueda ejercer lo que consideramos un derecho con mayúsculas el derecho al retorno elkarrekin podemos taldetik aho batez lortu dugun akordio honen jarraipen sutsua egingo dugu

y eso pasa indiscutiblemente por incluir medidas efectivas que partan de solucionar lo que no funciona y en nuestra opinión también será necesario en función de lo evaluado

pero también a las jóvenes que no encuentran futuro en euskadi aunque no sean ingenieras

a las niñas y niños que crecen sin conocer sus raíces o que al menos crecen lejos de ellas o también a las curritas y curritos a cualquier persona que como yo misma se haya tenido que ir a algún país a trabajar en un bar a cuidar criaturas a limpiar casas o a cuidar de nuestras abuelas

hacen muchas mujeres en definitiva medidas para que cualquiera que se haya marchado tenga un apoyo público para volver si este es su deseo porque aquí no sobra nadie

y es en el mismo en el que no tenemos ninguna pega sino que manifestamos alegría de dejar elementos a un lado para conseguir construir en lo común quiero acabar agradeciendo de nuevo la generosidad de todos los grupos porque ha sido fácil se ha enriquecido la propuesta y hoy la compartimos ahí se demuestra cómo ha habido voluntad por parte de todas para llegar

muchas gracias señora presidenta lehendakari miembros del gobierno señorías buenos días a todos

traído este debate y fundamentalmente quiero agradecerle el interés que ha puesto en que lleguemos a un acuerdo unánime todos los grupos de la cámara y además como ya ha desgranado los puntos del acuerdo pues poco más me queda que decir entonces me van a permitir que haga un poquito de historia un poquito de historia porque creo que el problema

que ponen encima de la mesa un problema real un problema muy importante que tenemos en nuestra comunidad

esto no ocurría antes si echamos la vista atrás hace cincuenta o sesenta años

si no cientos miles de personas diariamente que venían aquí a trabajar que venían de otras partes de españa de otras partes del mundo que venían aquí a trabajar porque lo nuestro era un hervidero de puestos de trabajo venía mucha mano de obra

muy cualificada porque era necesario para las grandes empresas que ya se habían instalado y estaban creciendo a un ritmo impresionante y para las nuevas que se creaban

generar nuevas casas nuevos edificios nuevos lugares donde esas personas pudieran vivir y trabajar crecieron empresas de servicios y pequeños negocios que prestaban sus servicios perdón la redundancia a todas esas personas nuevas que venían a vivir

se montaban en trenes en esta línea de ferrocarril de madrid irún y a la altura de gipuzkoa se bajaban del tren muchas personas que venían de otras partes de españa

en el andén no tenían nada no tenían una oferta de trabajo no tenían un plan de desarrollo personal nada

tenían un puesto de trabajo en pocos meses una vivienda a su disposición y podían traer a su familia todo este crecimiento fantástico

no tuvo que gestionarlo lo hicieron nuestras otras instituciones las diputaciones los ayuntamientos nuestras instituciones locales pero bueno gestionar las cosas bien cuando van muy bien es más sencillo

económicas y dejamos de crecer a ese ritmo pero no obstante teníamos un músculo suficiente y supimos

a vivir aquí porque seguíamos generando riqueza generando buenos puestos de trabajo

para poder seguir moviendo todas esas industrias y que fuéramos punteros que fuéramos un motor de la economía

el más grande eso se truncó más adelante llegó el terrorismo de eta y cientos de miles de personas se fueron de euskadi porque aunque tenían trabajo

y ahí nuestras instituciones poco o nada hicieron para que esas personas retornaran era muy difícil hacer una oferta para que esas personas pudieran volver cuando el ambiente seguía siendo irrespirable para ellos y la causa por la que se habían tenido que marchar pues seguía encima de la mesa

atractiva para volver y se llevaron a sus familias y en muchos casos se llevaron sus empresas y sus negocios

que es diferente el origen es distinto hoy resulta que es que nuestros jóvenes se marchan

y a otras partes del mundo porque están muy cualificados la mayoría de los que se van son los mejores no evidentemente las mejores personas sino sí

están perfectamente bien cualificados y no encuentran un encaje un desarrollo para su vida personal y profesional en euskadi y entonces

deciden marcharse y los datos están encima de la mesa nuestro paro juvenil es muy alto y sobretodo entre los que encuentran un trabajo aquí la precariedad de esos contratos es terrible

que todos los que quedan aquí sean los de segunda categoría se marchan fuera se marchan fuera y

fuera del país vasco y perdemos una gran oportunidad

mucha riqueza iban a generar mucho bienestar iban a dejar aquí a sus familias y así continuaríamos siendo

quizá ya en estos momentos no lo somos tanto como lo fuimos

hace ya unos años y el empleo público tampoco es bueno la precariedad en el empleo público es altísima tres cuatro de cada diez empleados públicos vascos son interinos

quiere desarrollar su carrera profesional su carrera personal en el ámbito del empleo público si no tiene el atractivo de la estabilidad

porque si algo es atractivo del trabajo como funcionario es la estabilidad si uno no tiene eso no tiene esas posibilidades y

nuestra función pública en todas las instituciones es altísimo pues toda esa gente se marcha y ante eso qué es lo que hacemos me parece que no estamos haciendo nada creo que los datos que no voy a repetir que nos ha puesto encima de la mesa la señora guanche de esos programas de retorno son ridículos son absurdos o alguien no tiene interés

o alguien no ha entendido que esa gente ha necesitado marcharse que no lo ha hecho por su voluntad

no tenían oportunidades por eso el acuerdo que hoy firmamos y suscribimos todos lo que hace es que se solicita a nuestras instituciones

a que miremos hacia dentro qué está ocurriendo para que euskadi no sea atractiva para muchos jóvenes por qué nuestros jóvenes o muchos de nuestros jóvenes no encuentran una oportunidad de trabajo de desarrollo pleno personal y profesional para

hacer su proyecto vital en la euskadi en la que vivimos todos porque ese es nuestro futuro ese es el gran problema esos son

a nosotros a los primeros puestos en todos los niveles de europa y ellos son los que van a tirar del carro de nuestra economía sin ellos no somos nada y nos convertiríamos en un país de tercera

que miren cuál es el problema qué es lo que ha ocurrido por qué los empleos buenos los empleos atractivos no los creamos nosotros no los crean las empresas que tenemos

de las miles de empresas de cataluña que se fueron por la crisis de los independentistas catalanes

una o ninguna de las miles de empresas que han huido de gran bretaña del reino unido por el brexit cuántas han venido a instalarse a euskadi

porque no somos atractivos eso es lo que hay que mirar ese es el verdadero problema el análisis que pedimos que haga el gobierno vasco

no somos atractivos para terceros para los que tienen que venir de fuera y para que los nuestros se queden aquí porque es que antes

se marcha de aquí a este paso nos podemos convertir en un país de viejos y eso es malo para todos por eso

y esperemos que esta vez el gobierno sí haga sus deberes mire para dentro y tome medidas urgentes para paliar este problema muchas gracias

que ha fracasado el plan de retorno juvenil pero que aún y todo volvía a contar con uno coma setenta y siete millónes convocatorias que acogieron a siete personas que no es más de un cinco por ciento del total de lo que se planteaba como objetivos aun y todo según el observatorio de migraciones ikuspegi la media anual de

de jóvenes de entre dieciocho y treinta y cinco años es un dato que para nada se refleja en cómo está respondiendo o cómo se está respondiendo

en el de ayudas al que hacía mención como

retorno juvenil o el propio landhome beraz edo

denoi bueno vamos con la propuesta el acuerdo conseguido en esta cámara en torno al retorno de las personas

yo creo que todos hemos compartido que la salida de capital humano o población tanto muy cualificada como con otra cualificación con distintas formaciones

con distintas aspiraciones porque no todos han salido por los mismos motivos aunque mayoritariamente es cierto que salieron en busca de oportunidades

mejores y más adaptadas no encontrándolas en su país como ha ocurrido en otras partes y durante tanto tiempo ya desde la salida de la crisis entendemos que la enmienda transaccionada finalmente lo que da respuesta es a la necesidad primaria es múltiple es diverso y no es uniforme hay unas personas muy cualificadas que a lo mejor son las que cuadran con algunos de los planes en marcha

con otras formaciones con otras aspiraciones además incluso en su propio proceso vital que puede pasar por no retornar o no retornar

que la enmienda presentada por eh bildu centró muchísimo el debate en el sentido de partir de un diagnóstico de cuál es el grupo de personas ante el que nos encontramos y que ese grupo con la participación

instituciones interpeladas que no solo es el gobierno vasco sino que pasa desde el gobierno de españa a los propios ayuntamientos sean los que aborden

cuáles son sus características cuáles son sus necesidades y cuáles son sus demandas era principal porque si no incluso los propios planes su optimización su mejora e incluso a la hora de los recursos que le son destinados no podrán hacerse

un tema que a todas nos ocupa y nos preocupa pero además vamos a conseguir

una actuación o una acción determinante la del diagnóstico que puede parecer lo menos en cuanto a las medidas de solución pero es lo más porque es la mejor manera de acertar a la hora de encauzar esta solución tanto de mejorar los planes

acometer otros en colaboración con otras instituciones

no son una mercancía para nadie las personas que se van o las que vienen y el valor humano lo compartimos todas

de vuelta eso es así habrá que acertar la mejor manera de garantizar esa vuelta ya he dicho cuál era nuestra posición respecto

esta iniciativa y a cómo el diagnóstico es uno de los mayores logros del consenso que hemos llegado hoy pero también creo que hay otro principal

cuando vuelven a euskadi tienen que tener plenitud de derechos y obligaciones como toda la ciudadanía vasca puede ser que tengamos que ajustar

nuevos planes de empleo que hemos aprobado recientemente y con el máximo consenso también respecto al empleo juvenil con otros paradigmas que podamos

que tenemos que ostentar todos en las mismas condiciones lo que ocurre para las mujeres que sufren violencia machista

antes y después de que vuelvan lo que ocurren para las personas con menos recursos

también tendrá que ser el acceso a las prestaciones y servicios públicos de esa euskadi que hemos creado entre todos y todas y a la que estamos esperando que vuelvan ellos

es una actuación o una medida política acertada que ayudará a optimizar esos planes que nos ayudará también en las políticas

a la hora de perfeccionar los servicios públicos y prestaciones que se da a las personas en euskadi también a los que vuelvan con nosotros y nosotras y felicitarme

se ha dicho antes de todos los grupos a la hora de llegar al consenso gracias eskerrik asko romero

existen diversos motivos para la emigración no todos los casos se deben a la falta de empleo o de oportunidades en euskadi entendemos

ante las que nos encontramos y en ello está trabajando el gobierno vasco vistas las pocas personas

de forma experimental en el año dos mil quince este año dos mil diecinueve no se convocará el departamento dirigido por arantxa tapia ha encargado ya

y conseguir que llegue al máximo de personas que pudieran estar interesadas en retornar y que vuelva ese talento a euskadi respecto a los programas de retorno juvenil del departamento de empleo y políticas sociales

han dado algunos datos aproximadamente un sesenta por ciento son las personas activas

de lanbide que pueden inscribirse en las ofertas según datos del departamento a día dieciséis de enero de este año podemosek oinarrizko ekimenean

ocurrir que quien mucho abarca poco aprieta y

para las mujeres víctimas de violencia de género que quieran regresar y este último colectivo

por supuesto que debemos de seguir mejorándolo pero no solamente a través de los programas de retorno por eso en el punto tercero de la transaccional solicitamos

preguntas que puedan aclarar esta situación porque entendemos que para poder mejorar y actuar hemos de tener un conocimiento previo

solicitaban también en la iniciativa original medidas de tipo social para los emigrados acceso a salud vivienda o mecanismos de protección social en este país

existe el derecho subjetivo a la vivienda y los mecanismos de protección social son los más desarrollados del estado e incluso podríamos decir que de europa toda persona

podrá acceder a dichas prestaciones y o servicios por lo tanto

por medio de los programas que impulsan y apoyan el retorno ados egon gaitezke pertsona hauek bueltatu nahi badute euren buelta horretan jaurlaritzak

muy rápido y solo una cosa por esto de aclarar

de lo mismo porque a veces llegamos a acuerdos pero luego parece que estamos hablando cada cual de lo suyo en la propuesta

propuestas sobre colectivos concretos que parten de análisis más amplios que no abarcan solo la comunidad autónoma independientemente de eso sí que

ahora existen dos programas que están dirigidos a dos colectivos muy concretos de personas que no están funcionando

y ya está dicho esto hay todo un grupo de personas

aquellas que ni son grandes talentos o que no encajan en un grupo de edad específica

y que son las que generalmente pueden encontrar mayores dificultades al volver es por eso nuestra insistencia no obstante

creo que es importante que evaluemos para que sepamos adaptar mejor las políticas públicas y que lleguen a todo el mundo pero sin olvidarnos

a quien se ha marchado sin querer y a quien no cuenta con herramientas para volver besterik ez mila esker eskerrik asko guanche andrea ruiz de arbulo